hausnarketa egin nahian eta partekatu nahian nator gaur una parte de la respuesta a la pregunta de hoy la recibimos el propio martes a través del señor erkoreka que nos dijo que la ciudadanía de araba bizkaia y gipuzkoa en estas elecciones ha refrendado su gobierno y su alianza una lectura algo simple

hausnarketarako tartea ematen duenik ezin ukatuko dugu no quisiera creer que para usted no es no sabiendo que el inmovilismo del sistema español es irresponsable

zioen cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí

cualquier atisbo de vasquismo para gobernar navarra era algo que le

con una relativa buena salud el partido socialista siempre respondió muy bien y fue razón de estado lo que pasa que luego las cosas cambiaron

yo creo que en todo caso hay que seguir mirando al dinosaurio eskerrik asko iriarte anderea denbora agortu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

tenemos por delante elecciones municipales forales y europeas autonómicas en algunas comunidades el mapa de representación es el que ha cambiado el resultado electoral podría hacer posible un gobierno en el estado pero

el resultado del domingo debería hacer posible un tiempo de diálogo negociación y acuerdo para afrontar soluciones políticas en el estado y ustedes así lo plantean lo único que me permito sugerirles es que no supediten su actitud política aquí

que madrid no sea excusa para no alcanzar acuerdos aquí en euskadi aquí la puerta

la tienen abierta de par en par no perdamos ya más el tiempo y demos un paso adelante

la opción es diálogo negociación y acuerdo empezando por euskadi y con la mirada puesta en relación

egoerari buruz a principios de abril

principalmente por las incertidumbres de la economía internacional las mismas por las que nosotros mostramos nuestra preocupación en nuestra última pregunta y que usted despachó

más o menos a la vez también supimos que un fondo de inversión británico se había convertido en accionista mayoritario de euskaltel con las dudas y con las incertidumbres que esto genera

de una línea propia con dinero público aste hauetan ere

con los indicadores que le hayan preparado probablemente pero la realidad es que creo que no tiene ningún plan ni para fortalecer

ni para generar empleo de calidad y valor añadido ni tiene un plan para consolidar la protección que las instituciones deberían dar a las personas en época de crisis

y créame señor urkullu que ante los riesgos evidentes de desaceleración

lo que debería de estar haciendo su gobierno es preparar a la sociedad vasca para lo que pueda venir argi dago zure politika industriala eta

egiten ari zaretela y por lo tanto está usted condenando a la mayoría social vasca a vivir en la precariedad

ante este panorama como oposición no podemos callar estamos obligados a señalar que estamos ante un reto de país

tejido productivo y fortalecerlo y cómo diseñar un mejor sistema de protección social en el que nadie se quede atrás si vienen mal dadas y por eso también yo le quiero recordar

la sociedad vasca ha votado mayoritariamente opciones progresistas y que cualquier acuerdo que tenga usted con la oposición debe partir de ahí

mire estas cuatro semanas la evolución de la economía y el empleo ha sido positiva crecimiento del dos coma dos por ciento y recuperación recuperación de la industria se crea empleo y el paro

continuemos la tendencia señor martínez se ha reunido la comisión mixta y se ha materializado la transferencia de la ap sesenta y ocho tenemos un calendario y un plan de transferencias

del gobierno español con el autogobierno reconocido por otra parte se ha publicado el estudio

en el ranking de excelencia educativa que elabora la asociación de profesionales por la ética añadiré otro más entre las cosas que han sucedido este mes

o no sé si aplica la lectura a lo que es su actitud aquí de oposición junto con el partido popular en todo caso el resultado electoral señor martínez en euskadi ha sido nítido

pero esta sociedad quiere seguir avanzando y no está dispuesta a dar marcha atrás

sino lo que podemos hacer en los próximos meses y años y la cuestión es qué aprendizaje extraemos para el próximo futuro de lo que acaba de ocurrir este domingo señor martínez yo he tomado nota de lo que usted ha declarado en campaña de cara

entre elkarrekin podemos eh bildu y el partido socialista de euskadi de cara al futuro tome usted nota también de nuestra disposición presente y reiterada a alcanzar acuerdos en relación a cuestiones que he presentado en esta misma tribuna acuerdos que por otra parte también con ustedes hemos alcanzado y no hablo insisto de adhesión sino de negociación con voluntad de acuerdo por todas las partes mire la

está abierta directrices presupuestarias plan de empleo y reactivación apoyo a personas emprendedoras lanbide formación dual

agencia de internacionalización agenda digital estrategia de parques tecnológicos

programa ambiental dos mil veinte plan contra el fraude fiscal estrategia socio sanitaria

renta de garantía de ingresos estrategia contra la brecha salarial análisis de la reforma fiscal si quieren ustedes sumarse y sumar tienen la oportunidad de hacerlo si según ustedes podemos ser capaces de entendernos en madrid no sé por qué aquí en euskadi la comunidad más cohesionada

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hoy que parece que está tan de rabiosa actualidad como es la cuestión de los pactos

que pone de manifiesto tres cuestiones que van muy al pelo de esta cuestión primero que cuando existe voluntad real de acordar hay capacidad para acordar entre diferentes porque la ley de vivienda fue aprobada

de tradiciones muy diferentes como fue el partido socialista de euskadi eh bildu y upyd segundo que es más importante el para qué que con quién y tercero que incluso que hay gobiernos que en minoría son capaces políticas progresistas en este país y creo que este gobierno lo es y en este sentido la ley de vivienda es una perfecta base para poder aplicar políticas progresistas y parafraseando a un medio de comunicación a nivel

que hay un órdago en euskadi en referencia al alquiler social porque el gobierno vasco va a destinar está destinando

millónes de euros en el periodo dos mil dieciocho a dos mil veinte para promocionar viviendas social lo que supone también una evolución en cuanto también a la tendencia social del incremento de las solicitudes de viviendas de alquiler porque de sesenta y cuatro mil solicitantes de vivienda en euskadi

realizan una demanda de alquiler por tanto siguiendo esta tendencia

porque incluso el ministerio de fomento lo ha tomado como ejemplo y ha invertido la tendencia tradicional de los últimos años de destinar más dinero a la promoción

en venta para destinar más recursos a las viviendas de alquiler por tanto son políticas que permiten la emancipación de los jóvenes que permiten la cohesión social

que permiten que aquellas personas que menos recursos tienen tengan oportunidades de iniciar y de consolidar su proyecto de vida y en este sentido

porque nos resulta de interés conocer los planes que su consejería tiene al respecto de la promoción de vivienda destinada a las personas que menos

señor consejero de dinosaurio a dinosaurio del planeta de los dinosaurios que va a presidir pedro sánchez me gustaría saber cuáles son sus planes eskerrik asko eskerrik asko

es cumplir las disposiciones de la ley de vivienda es lo que estamos haciendo

de esta legislatura tanto en otros aspectos como la vivienda en alquiler como en el conjunto de las políticas relativas a la vivienda

a la hora de programar las promociones de vivienda protegida hemos tenido muy en cuenta de orientarlas preferentemente hacia el alquiler en primer lugar porque así lo establece el marco legal definido por la ley del dos mil quince

y además porque así lo determina la demanda de la ciudadanía como usted comentaba aquí de las sesenta y siete mil ochenta y tres unidades familiares demandantes de vivienda en el registro de etxebide

solicita una vivienda en alquiler y más concretamente de alquiler social porque el ochenta y dos coma seis por ciento de esas unidades familiares tienen unos ingresos entre tres mil y veinte mil euros anuales una cantidad que como puede suponer

por todo ello desde que comenzó la actual legislatura la actividad promotora del departamento se ha orientado a la vivienda en alquiler una dirección que queda rotundamente reflejada en las acciones y objetivos marcados en esta materia por el plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

anuales de los recursos que vamos a disponer este año

y un veintidós por ciento corresponde a actuaciones de rehabilitación urbana

descontando la rehabilitación a políticas de alquiler vamos a dedicar el noventa y dos por ciento de gasto directo del programa de vivienda en esta línea

que se prevé iniciar en el presente ejercicio novecientos cincuenta lo serán en alquiler hace ya años que las viviendas en venta desaparecieron totalmente de las actuaciones directas del departamento y en el caso de visesa desde dos mil dieciséis

reorientando su actividad de forma decidida a la vivienda en régimen de alquiler

a su trayectoria anterior de modo que el cincuenta y cinco coma seis por ciento de las vivienda calificadas desde entonces por esta sociedad pública han sido en régimen de alquiler protegido comprenderá

un mínimo de cuatro años desde que se dispone el suelo hasta que se entregan los pisos y sobre todo cuando existen compromisos contraídos con ayuntamientos y otras entidades que hay que cumplir

y causar un grave quebranto en las cuentas públicas sin embargo puedo anunciarle que en su último consejo de administración celebrado

se informó que a partir de junio del próximo año dos mil veinte visesa ya no calificará nuevas promociones de viviendas en venta se limitará

en otras palabras cuando la ley de vivienda cumpla cinco años el cien por ciento de los pisos que se califiquen para su promoción desde la iniciativa pública serán en alquiler

gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros señora consejera buenos días señorías la ley dos barra dos mil diecinueve de catorce de febrero de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio dos mil diecinueve

las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones que figuren nominativamente asignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para dos mil dieciocho esto que es claro conciso y que no tiene porqué generar ninguna duda está suponiendo una auténtica tortura para los destinatarios de las partidas de su departamento especialmente para los comerciantes a algunos se les dice que no van a recibir la partida que no hay dinero vayan ustedes buscando convocatorias

en su actividad con otros es un puro regateo

algo más de lo que inicialmente te ofrecían sin embargo

y así lo venden en sus juntas resumiendo señorías

por otra parte están ofreciendo desde la consejería ayudas para estructura de asociaciones de comercio

no existía en dos mil dieciocho y nosotros nos preguntamos qué partida soportará tales aportaciones y

estas aportaciones señora consejera en la respuesta por escrito que nos daba sobre partidas

y cuáles no hay tres partidas y no son ni una cosa ni lo otro han desaparecido no están

catorce por ciento del presupuesto de comercio señora consejera

qué es esto se ha aprobado en consejo de gobierno también

sin dotación suficiente en el presupuesto prorrogado y señora consejera nos preguntamos qué criterios utiliza su departamento para ejecutar las partidas

qué criterios siguen las ampliaciones de dotación suficiente y a qué partidas

gracias presidenta egun on guztioi en el texto de la pregunta que usted ha registrado a mi departamento señora

para ejecutar las partidas prorrogadas en el ejercicio dos mil diecinueve pues bien efectivamente en este caso partimos de un proyecto de presupuestos del ejercicio dos mil diecinueve

un proyecto que contaba además con una alta satisfacción por parte del sector lo que hacemos desde el departamento de turismo comercio y consumo es adaptar el contenido presupuestario dentro del marco de la prórroga a los programas que el departamento entiende que deben de priorizar

de comercio y turismo y el plan estratégico de turismo comercio y consumo por tanto utilizamos los mecanismos

para adaptarnos a los programas y contenidos del departamento y lo hacemos atendiendo a nuestros ejes prioritarios
ese es nuestro criterio muchas gracias eskerrik asko pérez anderea

señora consejera tan difícil le resulta cumplir la ley yo

resulta ejecutar las actualizaciones de gasto destinadas

en los presupuestos de dos mil dieciocho tan difícil les resulta tan imposibles están perfectamente identificadas y el expediente debe seguir en la misma sistemática que en el año dos mil dieciocho

es él toma y daca el trato

por qué lo que ayer no se podía ofrecer hoy sí por qué lo que ayer se ofrecía hoy no señora consejera no hay un criterio hay un trato

es bastante humillante para los comerciantes especialmente

es bastante humillante se lo han dicho se lo dicen ellos nos lo dicen a todos los grupos en esta cámara no se puede corregir esa actitud que sí que viene de atrás

y señora consejera qué me quiere decir que usted tiene un presupuesto b alternativo al de la prórroga oiga dónde está la transparencia nos puede pasar ese presupuesto b cómo lo va a ejecutar a su albedrio cómo lo va a ejecutar mire señora consejera

que se destinen las partidas tal y como fueron aprobadas y que fueron fruto de un acuerdo con los propios comerciantes

gracias presidenta como le explicaba anteriormente señora lópez de ocariz

sobre los que el sector mostró un alto grado de satisfacción pero tuvieron que ser retirados al presentarse la enmienda a la totalidad en esta situación

que adaptar en la medida de lo posible las consignaciones presupuestarias a las directrices de los planes directores y al plan estratégico consensuado con el sector para la promoción del comercio por lo tanto seguimos trabajando con los recursos que disponemos en nuestros ejes prioritarios

fomentar la digitalización y el acceso a las plataformas de venta online del pequeño comercio

así como el fomento de la formación de los consumidores entre otros usted ha hecho mención a las nominativas

planteó en el presupuesto del dos mil dieciocho también debe usted saber que lo que no se puede es hacer valer un presupuesto

pero además sí también le quiero informar que el importe de esas enmiendas

con lo cual tampoco entiendo las razones para esta intervención o para estar preocupada

y de nuestras políticas las cuáles serán oportunamente respondidas por lo que podrá disponer de toda la información al respecto no obstante también tengo que decirle que me sorprende el tono de su intervención y el fondo de las cuestiones que plantea

hemos manifestado desde el primer día nuestra total disposición para el diálogo

una disposición que le vuelvo a reiterar muchas gracias eskerrik asko

politiken ondorioz la situación es insostenible y me atrevería a decir

sin olvidar por supuesto la situación más que preocupante de los pueblos de treviño

treviño es más una carga hoy que una oportunidad para las diferentes administraciones y su declive también es nuestra responsabilidad las zonas rurales de toda la comunidad autónoma

en las ciudades no se ha dado aún con la fórmula mágica posiblemente no haya una fórmula mágica por eso nuestra interpelación de hoy en busca o para plantear una lucha común contra el despoblamiento que ya

pertsonak lehen eta bigarren mailan ipintzen ditu bizi lan edo disfrutatzen duten lekuaren arabera podemos decir que hay personas de primera que hay personas de segunda y segunda división diría yo que según donde vivan o donde trabajen y euskal herria bildu no va a permitir ni siquiera el olvido pero muchísimo menos el inmovilismo

se hace más urgente que nunca y medidas diría que urgentes también

a día de hoy no ofrece oportunidades no ofrece oportunidades en cuanto al empleo no hay trabajo hay poca industria y no nos podemos olvidar del primer sector que cada vez

un primer sector que efectivamente es el principal gestor del territorio productor de alimentos también pero bueno que se ve dirigido a una intensificación más acuciante con lo que

la misma solución para todos efectivamente no sirve cada territorio cada pueblo casa concejo

parte de ese territorio es un mundo es su obligación conocer cada realidad e intervenir en acciones concretas

no han sido efectivas se demuestra una vez más que no han sido suficientes ni para el primer sector por un lado porque no estaría como está

políticas de desarrollo rural muchas veces dirigidas y evaluadas de forma cuantitativa efectivamente tanto en dinero en presupuesto como en rendimientos que desde luego no han sido los esperados pero

que hubiera tenido desde luego creemos que otras consecuencias el desarrollo local tiene que ser endógeno tiene que surgir de los pueblos tiene que surgir de las personas que viven y trabajan allá porque de otra manera

hoy dirijo mi intervención a usted al señor urkullu directamente porque nos parece que esto es una cuestión de país y que la coordinación de todos los departamentos del gobierno

pero sobre todo es urgente para frenar esta situación me atrevería a decir que hay que ruralizar al gobierno que hay que ruralizar las administraciones

para que se pongan en el lugar de quienes sufren en primera persona las desventajas

yo diría que altamente desfavorecidas la euskal hiria del futuro no tendrá sentido sin el euskal herria o euskal lurraldea como quieran creemos que ese es el camino y desde luego ahí vamos a encontrarnos si todas las políticas salen desde la ciudad salen desde

porque el desequilibrio territorial es evidente aquí en araba es donde más evidente es y por dar tres datos concretos el espacio agrícola es un treinta y dos por ciento

a esto se le llama desequilibrio territorial un desequilibrio al que no tenemos más remedio

es fundamental compensar los desequilibrios poblacionales sí socioeconómicos claro pero cómo no los de servicios proponiendo ratios flexibles me atrevería a decir que ratios rurales

adaptados en temas como educación servicios básicos

sin eso para nada pensemos en buscar trabajo voy a dar un ejemplo porque los que vivimos todos los días en el medio rural pues sabemos

pero no quiero ser pesimista si no hay arraigo en un pueblo

pero habiéndolo difícilmente también no quiero que mi intervención hoy sea negativa esta es una interpelación positiva es proactiva además propositiva creo y desde luego la hemos traído con intención de que sea compartida porque entendemos

del medio rural vasco debe salir de un pacto de país no puede ser de otra manera tiene que pasar por encima de partidismos porque si no

eta ahulguneak indarguneak baino gehiago arazo asko eta ugariak dira quiero ser positiva pero me encuentro con problemas problemas de transporte problemas de acceso a la vivienda

asequibles es muy difícil vacías y accesibles casi imposible problemas de acceso a la tierra

problemas también para ir al médico tan sencillo como tener médicos alrededor sí sabemos que hay pocos habitantes que hay pocos votos en las zonas rurales pero eso no quita

que entender ese déficit como una inversión problemas también con los servicios sociales a los que habrá que diversificar y a los que habrá que impulsar definitivamente para que las zonas rurales la población en definitiva problemas generados por la centralidad de las capitales nos han vendido el éxodo rural como algo inevitable en esta civilización

porque muchos yo entiendo que los de arriba prefiera la gente estabulada como el ganado en urbes

mejor con gente moviéndose y trabajando mejor que gente moviéndose y trabajando en el medio rural porque

que en personas o pueblos diversos y sobre todo dispersos porque en el medio rural en nuestro entorno en la naturaleza está todo está nuestro pasado está nuestro presente pero también está nuestro futuro

no pongamos más gris en lo verde creo que bastante tenemos no lo llenemos de asfalto y hormigón porque eso no es desarrollo

y en el que vivir entendemos que hay que poner medios no van a ser fáciles pero hay que hacer atractivo vivir en el medio rural y eso no es fácil yo le preguntaría al señor lehendakari qué país ve de aquí

y desde luego cuáles son las medidas no tanto que se han tomado sino cuáles se van a tomar

el apoyo al medio rural en euskadi es una evidencia durante décadas y es obvio que las condiciones de vida han mejorado

y da la impresión de que le han despertado una necesidad de emulación con euskadi de alguna manera y se lo digo con rotundidad yo se lo digo claramente no se pueden equiparar situaciones que no tienen nada que ver tenemos un país con una tasa de densidad en la media europea euskadi es una comunidad cataloga como conurbación

en su conjunto por eso quizás como usted ha mencionado es el concepto euskal hiria

aunque efectivamente el medio rural tiene problemas no lo ocultamos problemas de desarrollo económico y de natalidad presentes también en las zonas urbanas

somos conscientes de las necesidades en el ámbito educativo sanitario

promoción económica y desarrollo rural tenemos que seguir mejorando me aceptará que nuestros problemas no son similares a los del medio rural y las zonas despobladas en el estado que han motivado de alguna manera la justificación también en la interpelación en la intervención anterior con este llamativo mimetismo que he denunciado

eta esan dizudan bezala horregatik gara zuk aipatutako euskal hiriaz euskal hiria no se entiende efectivamente sin su vinculación con el medio rural y el mundo pesquero no se entiende sin la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos en infraestructuras de comunicación vivienda sanidad o educación y me referiré por lo tanto a las actuaciones y respuestas que estamos dando comenzando por el ámbito de desarrollo económico mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones

a todos los pequeños pueblos de los tres territorios la inversión es de seis coma seis millónes de euros y euskadi se sitúa a la cabeza del estado en implantación de banda ancha

doscientos ochenta son fibra óptica hemos integrado las zonas rurales y litorales en los planes de desarrollo sectorial plan de comercio rural servicios sociales promoción cultural transporte rural plan de vivienda o educación en el medio rural se está desarrollando el plan

desde la red europea euromontana es destacable la colaboración con el foro rural mundial que está proyectando internacionalmente el medio rural y la agricultura familiar vasca hemos ampliado los instrumentos de desarrollo de las empresas del sector primario potenciando los instrumentos financieros avales prestamos y participación en capital

hemos ampliado la herramienta financiera sendotu con el objetivo de facilitar proyectos de inversión en actividades agrarias forestales pesqueras y alimentarias

que vertebra todas las actividades formación dirigida a la juventud para mejorar la profesionalización

agrarias desarrollamos acciones para la promoción del producto local agroalimentario hemos adecuado la marca

impulsamos la agricultura y ganadería ecológica profesionalizada invertimos en innovación a través de los institutos de investigación

fomentamos el desarrollo de actividades complementarias a través de la red de turismo rural que atrae a miles de visitantes y genera una actividad económica añadida y esta es una estrategia

el objetivo compartido es revitalizar el sector rejuvenecer las explotaciones agrícolas y contribuir a la mejora económica y el empleo en las zonas rurales

la apuesta decidida del gobierno junto a las diputaciones se ha materializado por ejemplo en el programa osoa de desarrollo rural dos mil quince dos mil veinte

nuestro objetivo es mantener un entorno rural vivo diverso y activo

a cualquier oportunidad convocamos anualmente las ayudas leader destinadas a la promoción y diversificación económica de los municipios rurales y estas ayudas son cogestionadas por el gobierno vasco y el grupo de acción mendinet que engloba a las dieciocho asociaciones de desarrollo rural de euskadi

y la diversificación económica de las zonas rurales y la mejora de su calidad de vida el total de ayudas destinadas al medio rural y litoral esta legislatura

y desde finales del pasado año venimos trabajando en la creación del ecosistema de emprendimiento e innovación social en el medio rural labean por otro lado nirea es un programa de colaboración público privada cuyo objetivo es contribuir a la reactivación del sector primario y la revitalización del medio rural y litoral

el papel de la mujer en octubre del año dos mil quince este parlamento aprobó por unanimidad el estatuto de las mujeres agricultoras euskadi se convirtió en la primera comunidad en regular la situación laboral

nuestro objetivo es hacer más visible el trabajo de las mujeres agricultoras y promover su acceso a la titularidad de las explotaciones por lo tanto señora lópez de arroyabe la implicación del gobierno y de las instituciones públicas en materia de desarrollo rural es evidente del año dos mil dieciocho del año pasado la diputación foral de araba constituyó la mesa interinstitucional para fomentar el equilibrio territorial y ya que

en esa mesa interinstitucional toman parte cinco departamentos del propio gobierno vasco eskerrik asko eskerrik asko

eta eskerrik asko urkullu jauna después de toda la batería de medidas que me ha dicho que han tomado yo le he pedido bueno ya vale y ahora que vamos a tomar

la respuesta creo que se da por hecha no incluso diría que son tantas las medidas que no han sido efectivas porque hemos metido tanto pero

solo faltaba que no solo faltaba que no pero me dice que tengo una imagen tremendista no no ya le aseguro yo que no es una imagen tremendista es una imagen absolutamente real

en treviño ya que decir no es una imagen tremendista vivir en el medio rural hoy es militar en el medio rural y

prometo que hay muchísimas dificultades que ni con todo esto que usted nos ha vendido se han hecho frente me dice usted la banda ancha por ejemplo

yo no me quedo y como yo tantas personas que están marchándose porque tienen mayores a los que cuidar niños a los que dar educación les falta transporte les falta servicios sociales

porque el kilómetro cero también es cuando podemos trabajar en unas zonas cuando no tenemos

creo que ese no es el debate de hoy pero bueno la agricultura familiar poco a poco va desapareciendo poco a poco va desapareciendo vamos desapareciendo

en las ciudades lo he dicho además de nada nos vale de nada nos vale es un turismo que viene y se va no estamos creando riqueza de momento no estamos creando riqueza necesitamos que la gente se quede y bueno también ha mencionado usted todas las estructuras que tenemos efectivamente ya se lo he dicho tenemos que

desde eh bildu ya se lo he dicho creemos que es un éxito traer hoy este debate aquí ponerlo a partir de junio

qué es el territorio que queremos para qué lo queremos o para qué lo necesitamos tan sencillo como eso

tenemos que ver y reconocer al territorio su valor su valor intrínseco su idiosincrasia sus espacios naturales que también los hay y desde luego al primer sector que es quien mejor sabe cómo gestionarlo pero yo pediría un paso más allá más allá de medidas concretas creemos que tenemos que dignificar lo rural

para eso se lo he dicho en la primera parte y se lo vuelvo a repetir ahora creemos que lo primero de todo la primera parte es que hay que ser conscientes de que hay un problema seguiremos mejorando eso quiere decir que el problema existe

y un plan estratégico viable activo y participativo tiene que salir de las personas que están allá viviendo no lo podemos hacer

debemos contar con esas personas que son los protagonistas que son las que viven en las comarcas quienes participan en los concejos quienes participan en los pueblos son quienes mejor nos van a decir qué hacer qué necesitan o qué les sobra y ya por último bueno pues creo que tenemos que buscar un consenso un acuerdo de país

éxito un acuerdo de país contra el despoblamiento sería una garantía de que vamos a hacer algo y me voy a permitir estos micrófonos y esta mesa hoy para decir que yo voy a poner encima de la mesa un sueño y se lo he dicho en la primera pregunta

me voy a plantear hacer tener un sueño porque creo que cuando soñamos los creemos

pero que cuide la tierra que la respete que de oportunidades a las personas que allá están que aquí están

que priorice las políticas públicas es que de otra manera no se puede entender y

usted tenga una imagen catastrofista sino que proyecta esa imagen catastrofista en todo caso

o la apuesta por lo que es el desarrollo económico el desarrollo integral de lo que es el medio rural en su conjunto mire hace más de treinta años

vasca de desarrollo rural y en estos momentos tramitamos la nueva ley tal y como establece nuestro programa de gobierno y esta ley se adaptará a las transformaciones socioeconómicas en el ámbito de la unión europea es verdad he citado en mi primera intervención el ámbito económico y yo creo que las medidas son realistas

a evaluarlas y a seguir también contrastándolas para

hasta ahora se hayan puesto en aras a lo que es mi imagen de cara a veinte años treinta años y de que euskadi sea un territorio de excelencia también en el ámbito rural

y recogen la recomendación de preservar los núcleos rurales favoreciendo la rehabilitación y el mejor aprovechamiento de la edificación existente y nuestro objetivo es tratar de ayudar a que no se produzcan

favoreciendo en su caso la concentración en los núcleos urbanos

por vivienda y este programa se desarrolla en colaboración con los entes locales además

la pervivencia del mundo rural y una gestión del territorio más equilibrada me refiero por ejemplo también al ámbito educativo que ha mencionado usted un dato

los que dan respuesta a las necesidades de educación infantil y primaria

hablamos de centros rurales el noventa y cinco por ciento de ellos de titularidad pública la evolución del alumnado no habla

sino de estabilidad en los últimos tres cursos en los últimos tres cursos

en el ámbito de salud por ejemplo la ordenación sanitaria contempla ciento treinta y cinco unidades de atención primaria en cada uno hay un centro de salud

consultorios en diferentes municipios hasta totalizar trescientos treinta y uno centros de salud y consultorios periféricos beraz bai landa

la ope del segundo proceso selectivo unificado para proponerles entrar en la bolsa de trabajo unificada y concretamente habían suspendido las pruebas de capacitación física y la prueba de entrevista

y a estos candidatos les han propuesto una especie de repesca han
organizado un curso de recuperación bajando de nivel bajando la calidad para esquivar una prueba que entonces no habían superado yo lo que le quiero preguntar a ver si esto lo considera adecuado eskerrik asko eskerrik asko

departamentuaren aurreikuspen faltarengatik eta udal askoren aurreikuspen faltarengatik y no es lógico porque hay alternativas pero ustedes las están obviando y además las están boicoteando las están obviando porque muchos ayuntamientos prefieren hacer sus propias ope

porque la ope unificada de arkaute produce municipales con el mismo troquel que

producción aunque la insignia sea una o sea otra y porque los ayuntamientos al menos los de eh bildu

y es su derecho además porque quieren hacer procesos de elección con apego a las necesidades del propio pueblo a su propio entorno y mi pregunta es un aspirante de santurtzi dónde presta mejor el servicio en su zona en la zona que conoce en la zona que controla

es lógico que un aspirante de laudio acabe trabajando prestando el servicio municipal en irun pues yo creo que no porque la

de proximidad por definición y la cuestión es tal vez cómo interpretamos este principio con una oferta centralizada gestionada por lo que está convirtiendo usted arkaute en una agencia de contratación que adjudica recursos hechos

o si precisamente hay que atender a esas circunstancias diferentes y además con un proceso para readmitir

porque los ayuntamientos quieren hacerlos pero ustedes tienen que enviar representantes de arkaute a estos procesos de selección y no lo están haciendo está boicoteando

y lo que está bloqueando es estos procesos obligando a los ayuntamientos que querían hacer sus propios procesos a renunciar y a someterse a la ope unificada a su ope y le tenemos que decir que este no es el modelo que se ha acabado que no vamos a volver a recurrir a estas bolsas de empleo y que lamentablemente abriremos otra línea de confrontación con su departamento porque

señor arzuaga producción versus formación formación es lo que

de profesionales desde ese punto de vista también un poco

considero positivo mantener el compromiso de colaboración entre el departamento y los ayuntamientos vascos en el ámbito de la seguridad pública considero importante e imprescindible un compromiso que

facilitar a los ayuntamientos el poder tener personas personas muchas veces en

puntual y por otra parte facilitar la formación a los y las profesiones en la academia arkaute mire justamente en esta bolsa de trabajo de la que estamos hablando hay que proceden de ayuntamientos de eh bildu hay agentes que proceden de esos ayuntamientos por tanto boicotear para nada ahora usted estará conmigo en que planificar la formación y también el calendario formativo en la academia requiere

no tenemos una academia y unos recursos que puedan responder a demanda por tanto hemos considerado y así se ha considerado también con los ayuntamientos que la forma más

de ope de formación también unificada de manera que además los candidatos se ajustan a los perfiles exigidos para cada uno y por cada uno de los ayuntamientos respetando en todo caso esa autonomía municipal quiero decirle que en cualquier caso este acuerdo para crear esta

de la segunda convocatoria unificada de policía local y también personas que están en el proceso selectivo de la vigesimooctava

donde está el departamento pero además también está eudel está están
sindicados como por ejemplo ela eskerrik asko eskerrik asko

egun on guztioi voy a empezar citando una canción de la polla records no es la primera vez que lo hago pero es que los pollos aparte de estar de vuelta

una especie clarividencia que hace que mencionarles venga al caso muchas veces voy a eliminar las partes soeces de la canción que tratándose de la polla records se pueden imaginar que son más de una y de dos y voy a mencionar aquellas que tengan relación con el tema en cuestión decían aquello

políticas y económicas vascas con la cultura british y tenían una canción que se llamaba en londres decían si allí tienen a la thatcher

y si no funcionan los teléfonos se preocupan y espantados preguntan

meten en una misma estrofa algunos de los elementos centrales del problema del escándalo euskaltel

de la compañía los teléfonos porque es una compañía de telefonía

el centro de decisión de la empresa euskaltel porque sí señor lehendakari señora consejera el centro de decisión de euskaltel en estos momentos está ya

no es irreversible y no es definitivo pero el centro de euskaltel está ya

utilizando una retórica al uso pero un tanto ajada que las decisiones del futuro de euskaltel se van a tomar en algún oscuro despacho de londres pero no viendo que zegona el fondo propietario es una empresa de inversión al uso pues me imagino que no será un oscuro despacho sino un despacho lujoso con muebles de diseño y con unos grandes ventanales y vista a la city supongo que diáfanas tan diáfanas

que son hacer la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible con absoluta indiferencia del futuro del compromiso social de la empresa euskaltel

no es una cuestión de preferimos que sea vasca o preferimos que sea británica lo voy a explicar de una forma que todos ustedes lo van a entender a la perfección

igual me imagino que todos y todas las aquí presentes o una buena mayoría por lo menos queremos que dentro de diez años

con arraigo en el país que genere empleo aquí y que aporte al sector de las telecomunicaciones vascas

el único momento de la historia que le interesa a zegona de euskaltel es el momento en el que va a vender y el momento le interesa única y exclusivamente en referencia al precio al que va a vender sus acciones y si para eso tiene que romper con toda la filosofía de la empresa

incluso si para eso tiene que poner en marcha medidas que comprometan el futuro y la propia existencia de euskaltel lo va a hacer sin lugar a dudas

son absolutamente claras comprar arreglar vender esa es su divisa así lo dicen y así lo van a hacer y el gobierno preocupado el gobierno preocupado y el gobierno confiado yo algunas veces preferiría realmente que ustedes dijeran que están absolutamente de acuerdo con todo lo que está pasando en euskaltel saben por qué

me preocupa mucho más la sensación que están transmitiendo de que no hay nadie al volante de que no hay nadie al volante y eso sí que me preocupa prefiero a alguien equivocado al volante

ustedes como decía están preocupados ustedes dan bandazos ustedes esperan ustedes confían ya le dije al señor erkoreka que le voy a preparar un formulario para sus ruedas de prensa en las que aparezca siempre la formula estoy preocupada y confió de hecho se lo he traducido al latín para que lo pueda incluir como divisa solicitus

lo pueden poner en el escudo del gobierno vasco o si no en el recuadro donde estaba el escudo de nafarroa ahí pueden poner solicitus

y confía pero ya va siendo hora de que dejen de estar preocupados y de confiar y empiecen a hacer cosas oso argi dago zertarako datorren zegona

sobre el arraigo cuando sale una empresa a bolsa qué esperamos que vengan benefactores que vengan filántropos que vengan personas a apostar por el país o que vengan inversores que dan prioridad a la rentabilidad sobre el arraigo entonces por qué aplaudimos que se salga a bolsa no ha habido

la oposición a los pasos que se estaban dando ni lugar sobre la duda

por parte de los partidos que sustentan al gobierno en todo este proceso y repasaba intervenciones anteriores y veía que cuando reprochaba que los fondos

el previo a la salida a bolsa trilantic e investindustrial eran los fondos buitres

su identidad de fondos buitres como no lo hace zegona no lo ocultan es que si alguien invita a cenar a jack el destripador se puede esperar que va a acabar siendo la cena

en euskaltel salen a bolsa hacen el pelotazo y ahora vienen las quejas eta daukaguna da eta ezin dut

pueden decirme que el centro de decisión formalmente y el domicilio fiscal sigue aquí

y el tipo de decisiones que se pueden tomar aquí en euskal herria mirando

son diametralmente opuestas repito no es una cuestión de chovinismos es una cuestión de vinculación con el país es una cuestión de compromiso

es una cuestión de relaciones con los productores es una relación de prioridades a la hora de hacer inversiones aurre egin ahal diogu egoerari egoera dagoeneko

jaurlaritzak iragarri zuen funts publikoaren inguruan euskal herria bildu lleva años pidiendo un fondo vasco un fondo de inversión para evitar que las empresas vascas recorran el camino que ahora está recorriendo euskaltel porque no es la primera

cuando acb estaba en crisis se convocó la mesa del acero vasco señora tapia usted lo recordará

propiedad de capital vasco estaban brasileños estaban

en la mesa del acero vasco no había ninguna empresa de capital vasco y esto va a seguir siendo así si no se le pone coto y si no se le pone remedio

acordado en este parlamento dicen que somos pinza que somos destructivos que no proponemos nada hemen akordio bat egin genuen inbertsio funts horren inguruan iaz

que era una empresa cuyo arraigo no corría ningún peligro y ahora parece que tiene dudas a la hora de entrar en euskaltel cuyo arraigo ya está más que en juego eta

ni ha presentado el fondo han pasado no seis meses sino catorce

por qué no actúan con transparencia y nos lo cuentan por qué tenemos que estar mirando los periódicos a saber qué pasa con el fondo cuando hay un acuerdo y hay un plazo temporal para la constitución de ese fondo por favor señoras y señores del gobierno pónganse las pilas porque no está en juego su reputación o su buen nombre está en juego una empresa fundamental para el futuro de este país

por tanto vamos a decir que lo importante es ser un pueblo competitivo y tener empresas competitivas a partir de ahí vamos a centrarnos en el caso

que euskaltel dispone de un acuerdo que usted ha despreciado pero que desde luego un acuerdo alcanzado entre los accionistas que precisamente garantiza el arraigo de la empresa

que usted ponía en duda la salida a bolsa de una empresa bueno la salida a bolsa de las empresas de este país

se ha demostrado así en muchas en todas las empresas que son cotizadas en euskadi por tanto yo diría que no es malo que una empresa salga a bolsa en sí mismo y creo que este tema ya lo hemos debatido

del arraigo de euskaltel a lo largo del tiempo se han ido produciendo diferentes circunstancias desde su constitución

hasta la salida de la parte vamos a decir más pública en el año dos mil doce de la entrada de fondos de inversión e incluso de la salida a bolsa

se aprovechó precisamente esa salida para modificar los estatutos de la compañía con el fin de garantizar una serie de elementos fundamentales de arraigo

excepcionalmente elevado de aprobación de unos acuerdos que están ligados

y en esos estatutos que fueron considerados y aprobados por todos aquellos accionistas que se encontraban como accionistas en el momento de la salida a bolsa decían que

los definidores del arraigo eran el domicilio social sí el objeto social pero también el cambio de la posible marca euskaltel en euskadi la efectiva administración y dirección de la sociedad en euskadi concepto que además de la sede social comprende

pero además la celebración el mantenimiento de recursos personales el mantenimiento de centros de trabajo el mantenimiento de medios materiales y en definitiva

en euskadi así como la propiedad de la red de telecomunicaciones por tanto creo que ese arraigo está más que garantizado y dice expresamente la mayoría es excepcional porque la mínima necesaria para cambiar cualquiera de esos elementos de arraigo

es decir que accionistas que en su conjunto tengan el veinticinco por ciento pueden actuando de forma conjunta vetar cualquier cambio en los elementos de arraigo esto es

que lo tenga y desde el año dos mil cinco hasta ahora kutxabank ha ido modificando su participación hasta situarla

pero si aunamos a las acciones de kutxabank otras acciones participadas o de otros accionistas vascos teniendo en cuenta fondos de pensiones accionistas privados y demás se llega a ese veinticinco por ciento por tanto

no está en duda esas condiciones no están en duda es más de los accionistas presentes cuando se salió a bolsa cuando salió a bolsa euskaltel

el cincuenta por ciento de esos accionistas firmaron ese acuerdo luego yo creo que el elemento de arraigo definido además perfectamente está garantizado

al fondo de inversiones que en este momento ostenta la mayoría de ese veinte por ciento veinte por ciento no más es público como funciona un fondo de inversión sea este o sea otro y evidentemente en una parte es positivo

generar un crecimiento y le diría dos cosas más además de un fondo de inversión sí es cierto y es verdad que yo le he dicho en más de una ocasión que sería importante para el desarrollo futuro de esta compañía que existiera un inversor industrial como mínimo que garantizara

también tengo que decir porque usted decía otro elemento que es que los fondos de inversión siempre suelen decir la verdad no suelen ocultar sus acciones futuras o sus intenciones

que zegona como tal como fondo de inversiones ha mantenido diversos contactos con este gobierno

en los que nos ha ido transmitiendo de forma directa cuales han sido los pasos que iban a adoptar han sido claros y transparentes en su forma de actuar

su voluntad de mantener el arraigo de no poner en ningún momento en duda el tema del arraigo de querer crecer sobre

de hacer crecer la compañía de diversificar negocio y de diversificar actuaciones

y sobre todo un elemento muy relevante de no realizar no ejercer ningún tipo de imposición ni en la junta

elementos de acuerdo con otros accionistas mayoritarios que lleven a la compañía en la buena dirección hasta ahí en estos momentos es la forma en la que se está trabajando

que tal como ha entrado en un momento determinado saldrá sí es conveniente que exista

en algún momento de toda esta transición vemos en riesgo esa posibilidad de que el veinticinco por ciento no esté en las manos adecuadas evidentemente el gobierno tiene los instrumentos necesarios para poder actuar y para poder intervenir hoy

en dos mil doce cuando venden la red de fibra óptica y parte de las acciones

este dinero servirá para financiar políticas sociales lo que es la versión en política era el año dos mil doce de la gente que iba al vendo oro compro oro a vender las joyas de la abuela para a un gasto a corto plazo un error de libro desde una perspectiva estratégica

que el arraigo estaba garantizado porque kutxabank y el gobierno vasco todavía eran accionistas mayoritarios qué tiempos aquellos accionistas mayoritarios ahora me dice usted que con un veinticinco por ciento se va a garantizar mire

y el gobierno vasco pero luego kutxabank y los fondos pero siendo kutxabank y teniendo el control se amortizaron puestos de trabajo se externalizaron servicios esenciales de la compañía

a los proveedores se abusó de las subcontratas se liquidó el equipo ciclista

de los que hace historia eso siendo mayoritario kutxabank me quiere decir ahora que con un veinte por ciento kutxabank que además kutxabank se está carcajeando en nuestra cara porque cuando estamos pidiendo que incremente su porcentaje

de polémica kutxabank todavía está desinvirtiendo en euskaltel y lo que no ha hecho kutxabank con un cuarenta y nueve por ciento más un dos por ciento que le daba el control

que se cuece en la olla a fuego lento y ustedes quieren que no reaccionemos pero nosotros hemos denunciado cada paso y este es el momento de decir basta

que tome con determinación el volante y haga lo que le corresponde decía que tiene muchas aristas mi intervención pero básicamente tiene dos dos a las que no ha respondido

el arraigo de euskaltel y cómo y cuándo va a poner en marcha el fondo de inversión para garantizar el arraigo de empresas estratégicas y a veces usted me dice es que esto lo estamos haciendo ya sé que no es de su gusto

es verdad que tenemos modelos distintos pero es que a veces llegamos a acuerdos y esos acuerdos se supone que son una síntesis o un punto de encuentro pero si esos acuerdos no se van a cumplir explíqueme usted para qué llego yo aquí acuerdos con el partido nacionalista vasco y el partido socialista si llego acuerdos para pedir que se derogue la reforma laboral y cuando no se deroga pido que se hagan más cosas me dice no no es que hay un acuerdo

es que ya hemos hecho un acuerdo llego a un acuerdo para que se haga una hoja de ruta para poner en marcha un fondo de inversión estratégico en esta país y no se pone en marcha entonces claro ya no es que cuando tenemos modelos distintos porque tenemos modelos distintos y cuando llegamos a acuerdos porque luego van hacer ustedes lo que les da la gana

entonces entienda que yo estoy cabreado y he puesto sobre la mesa más allá de retórica más allá de decir que los acuerdos dicen no sé qué porque ya digo que con capital mayoritariamente vasco se han hecho tropelías en euskaltel y a partir de ahora se van hace tropelías y a usted zegona le puede contar

misa en latín que zegona lo que va hacer es revalorizar su inversión al máximo

y si el feo de zegona no cumple lo van a echar bueno es una compañía pequeña y muy peculiar pero es que esas funcionan así si no cumplen los accionistas lo que piden es revalorización de la inversión y si para eso tienen que

todavía más euskaltel lo harán lo harán porque esa es la vía que estamos siguiendo y usted dice que hay que invertir en las compañías y luego salir hombre a veces

y a veces hay que hacer inversiones con vocación de permanencia y con vocación de articular también

como tiene noruega claro y a mí también le genera problema es un gasto no

y no dicen que eso se detrae de políticas sociales esto es una garantía de futuro para el país y a una escala evidentemente mucho más modesta lo que pido es que se empiece a invertir en empresas estratégicas porque aunque a corto plazo hay que poner ahí un dinero

rentable y no es cuestión de crecer y de aplaudir cada salida a bolsa porque no es la única vía para obtener financiación no es la única vía pregunte usted a eroski

y con un buen arraigo en el territorio y con una buena cuota de mercado

no ha conseguido ser lo que es por zegona ni por ceos

y daba prioridad a ser consumidor de ese producto porque era un producto de este país
y porque redundaba en el beneficio de este país y si pierde eso ha empezado a perderlo todo eskerrik asko casanova jauna

volver a comentar que el principal atractivo de un país como euskadi un país pequeño desde luego para que una empresa se encuentre arraigada continúe arraigada y desde luego seamos capaces de atraer otras empresas porque lo tenemos que hacer

tenemos que atraer empresas que además sean innovadoras desde luego pasa porque tengamos un ecosistema competitivo un territorio competitivo y le hablaba de elementos de todo tipo que tenemos que continuar poniendo en funcionamiento y que están recogidos en el plan de industrialización de esta

cámara desde luego lo que no tenemos que hacer lo que no podemos hacer ni debemos hacer es retener empresas cuando no son competitivas porque lo único que estamos haciendo es

para crear empresas que son rehenes eso no nos interesa como país porque esas empresas ni son competitivas ni generan empleo ni realmente están generando economía y tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener otro tipo de empresas entre todos tenemos que conseguir que realmente una empresa como euskaltel continúe aquí

y continuar trabajando para que además de estar arraigada de generar desempleo de que ese empleo sea de calidad

todavía le falta es un desarrollo al servicio del tejido empresarial euskaltel nació sirviendo a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas pero tiene todavía una carencia en el ámbito empresarial que estimo que tiene que hacer frente y que en este momento en su plan de gestión y en su plan estratégico está

la labor de este gobierno será continuar apoyando para que eso sea una realidad

el fondo soberano noruego y se lo dije la última vez de dónde sale el fondo soberano noruego de sus recursos casualmente fósiles como usted bien sabe bueno ese es otro debate en el que tampoco estamos muy de acuerdo pero quizá

sacar de nuestro subsuelo algunos recursos fósiles que tenemos pues quizá pudiéramos tener ese fondo soberano pero si no va a ser imposible va a ser imposible y esta cámara además ha decidido que no

y usted me dice que están preocupados porque no hay nadie al volante

es bueno evolucionar muy bueno evolucionar reconocer errores y trabajar por la industria pero

desde que llegó la democracia a este país lecciones las justas y ya sabe usted con los conversos a la cola eskerrik asko eskerrik asko tapia

de alguna forma lo que es la reserva de la biosfera de urdaibai a nuestro juicio desde luego tiene que llevar los dos ámbitos

bien ajustados por supuesto pero tiene que llevar los dos ámbitos y tiene que cumplir tres funciones que consideramos complementarias conservar para proteger lo que son los recursos las especies tanto

una función de desarrollo a fin de promover un desarrollo económico y social de todos los ámbitos de todos los municipios que se encuentran en el entorno y

de formación de educación que permanentemente nos lleven a tener esa visión de forma conjunta

de ese programa de actuación que tiene el patronato lo que es el programa de armonización y desarrollo de actividades socioeconómicas lo que a través de diferentes planes sectoriales y es ahí donde

sectoriales y voy a hacer referencia a las actuaciones que ya se están llevando a cabo no las que pretendemos llevar a cabo sino cómo estamos llevando

todas las actuaciones que están recogidas en ese plan de desarrollo que hacen referencia como usted creo que comentaba a tener un espacio rural desarrollado

un sector turístico que avance también en la gestión estructuración y promoción exterior un territorio bien comunicado es decir con unas infraestructuras de transporte adecuadas

saque el mayor partido posible a los recursos que tenemos en ese momento trabajando de forma coordinada con los distintos niveles tanto desde el punto de vista de gobierno vasco como diputaciones forales y municipios implicados todo eso es lo que se ha recogido en el padas en los diferentes programas y planes sectoriales

hasta este mismo año desde el punto de vista de desarrollo rural

y en la mayoría de ellos suponen inversiones en equipamiento en infraestructuras y servicios púbicos y también apoyo a emprendimientos en diferentes iniciativas en conjunto se han apoyado ciento setenta y siete públicos y privados que han supuesto una inversión en toda la comarca de más de dieciséis millónes de euros entre el año dos mil siete y dos mil dieciocho de los cuales

se han desarrollado proyectos del tipo desde le remodelación del mercado de gernika

saneamiento depuración ecológica en merrua auzoa en ibarrangelu el saneamiento del barrio de zabala en la incorporación de vertidos del barrio de arratzu bueno

relevantes pero también proyectos privados asociados tanto al sector turístico como desde luego al sector de la transformación

también usted hacía referencia cómo se encuentra la flota en el ámbito

la flota de bajura por su condición de ser una de las actividades más rentables y respetuosas con el medio ambiente por la forma en la que se pesca en general en toda nuestra flota de bajura tiene dos áreas de interés o dos aéreas de actuación importantes

esa apuesta por esa red de bajura trabajando de forma sostenible y tratando además de apoyar nuevos proyectos relacionados con inversiones en mejora de condiciones de seguridad y salud de todas las personas que trabajan en esa flota de bajura

la dinamización de la actividad comercial en el puerto

de la flota a través de diferentes tipos de implantaciones de normalización en producción se han tomado cuatro diferentes tipos de medidas en primer lugar

incrementar los ingresos valorizando el producto que se descarga también en el puerto la tercera de las líneas es el fomento

y potenciar la distribución a través de comercios minoristas así como nuevas modalidades de venta otorgando mayor valor añadido a ese producto

la primera de ellas la atracción no supone recursos económicos a la segunda medida

la tercera de las medidas en el fomento de la calidad casi

tampoco ha sido un recurso excesivo y

en el conjunto de lo que es la potenciación de la distribución han sido

euros asimismo se ha tratado de modernizar

aplicando unos recursos para mejorar la situación de todos los barcos que están trabajando

y se ha puesto en marcha una nueva iniciativa que se dio a conocer el pasado año denominado

además de ese nombre que puede sonar un poco rimbombante lo que se pretende es trabajar de forma público privada con todo el sector

sectores más relevantes económicamente junto con la diputación foral de

y el gobierno vasco de tal manera que se ponga en valor todo lo que se está haciendo se genere una pesca sostenible más sostenible si cabe de lo que tenemos en este momento

de ciencia tecnología e innovación y que nos permita también mejorar la situación de los mares a través de una iniciativa concreta por ejemplo que se apostó este año de recogida también de plásticos en los

nos hemos centrado sobre todo en lo que es la transformación de la madera y

olatek es decir todos esos recursos forestales que tenemos en ese ámbito tienen su sector de transformación también ubicado en el mismo ámbito el turismo no corresponde

alimentaria junto con el departamento de turismo del gobierno tratando de optimizar los recursos y hacer que la reserva de la biosfera de urdaibai

como un espacio de turismo sostenible y que se adhiera a la carta de turismo sostenible europea en el ámbito energético desde el punto de vista de atención a los compromisos que aparecen

alternativas se ha mejorado el alumbrado de muchos de los municipios se han puesto en marcha nuevos proyectos de energías renovables en multitud de municipios en el entorno

de ámbitos donde desarrollarlo se ha puesto con la diputación foral de bizkaia

situado en gernika y continuamos con la intención de desarrollar el ámbito de muxika

lo estamos enfocando desde dos puntos de vista desde el punto de visto ferroviario y desde el punto de vista portuario en el puerto de bermeo mejorando todas esas instalaciones de tal manera que

máxima como hasta ahora cuando se renueve y se revise el nuevo programa que se está revisando en estos momentos eskerrik asko

bueno se ha referido usted señora consejera al conservadurismo me imagino que será el conservacionismo pero bueno no pasa nada

en que cuando se protege un espacio natural y más en una reserva de la biosfera sobre todo en una reserva de la biosfera precisamente porque lo que ha hecho valioso ha sido la unión de los valores naturales con la actividad humana lo que hay que hacer es proteger y desarrollar como he dicho pero

y eso es a veces lo que no entiende iba decir su partido la parte de su partido vizcaína digamos

pero coincido con usted en que es necesario un desarrollo económico porque de lo contrario se convierte en un parque temático o

funciona fenomenal pero el resto de actividades económicas no funcionan

revendiendo productos que se traen de mercabilbao porque

pero es solo un tres por ciento del empleo es solo un tres por ciento del empleo y ahí estoy incluyendo también la pesca entonces yo le voy a mencionar ciertas cuestiones que aparecían en la última evaluación que se hizo del padas del anterior padas que se hizo hace doce años ya dos mil siete pero que yo creo

casi ninguna es de las que en su momento la evaluación del padas ponía que estaban sin hacer y claro la mayor parte de ellas correspondían a su departamento es más en esta evaluación del padas ponían caritas verdes amarillas y rojas

correspondían a asuntos de su departamento por ejemplo en agricultura había un compromiso que a mí me parecía importante y que es la de incorporar el distintivo urdaibai de procedencia urdaibai en los productos agroalimentarios de calidad

poco se ha hecho en la pesca se hablaba de una apuesta por la flota de bajura pero es cierto que su departamento

la de cerco no la artesanal las cuotas de la artesanal cada vez son menores hemos hablado del verdel

son menores es cierto que usted ya me respondía por escrito que van atraer o están tratando de atraer flotas

pero es que las que han desembarcado en los últimos veranos son los pelágicos

que la pesca sea de todo menos sostenible y lo que tenemos que buscar es precisamente esa sostenibilidad

en los puertos se le pedía mantener el remolcador y construir la casa del mar y también se le pedía tener espacios para el servicio de los atuneros y el cabotaje

en industria se les pedía impulsar la eco industria obviamente no creo que se haya hecho nada y también y también esto sí es importante elaborar un plan específico de suelo y pabellones industriales porque efectivamente a raíz de las empresas que con la crisis han cerrado urdaibai tiene suelo industrial ahora mismo usted se refería a muxika no sé si se refería

lo que hay que buscar en urdaibai no es ocupar nuevos suelos sino reutilizar los suelos ya existentes y que sprilur se pueda involucrar en esa tarea y en el ferrocarril se le pedía el desdoblamiento de la vía

y el impulso del tráfico de mercancías por ferrocarril básicamente que yo entiendo que en esa materia tampoco se ha hecho gran cosa como le digo más allá de las actuaciones que ustedes no han hecho sobre el padas anterior a mí lo que me preocupa es las que van a impulsar de cara al próximo

como digo no todas las actividades son compatibles con una reserva de la biosfera si hay que desarrollar agricultura mejor ecológica si hay que desarrollar la pesca mejor la artesanal si hay que desarrollar el sector forestal mejor que sea un sector forestal sostenible y no ligado al eucalipto y a ser posible tampoco al pino

de los productos agrícolas ganaderos pesqueros y forestales que se producen en urdaibai

que sean infraestructuras sostenibles como el ferrocarril o energéticas como del autoconsumo de energías renovables lo que tenemos que buscar señora consejera

en un parque temático que no se convierta en el jardín que tenemos alrededor del chalet
porque eso flaco favor de le hace a urdaibai y a su población eskerrik asko

señor becerra estamos de acuerdo en que el padas tiene que trabajar desde luego desde el punto de vista cierto

pero no hacer solamente estrategia de conservación sino además de desarrollo social y desarrollo económico estamos de acuerdo que no cualquier cosa en cualquier lugar pero yo creo que el trabajo que se ha realizado desde el patronato de la reserva de la biosfera como todas las actuaciones

elementos determinados proyectos tanto a nivel de pesca como de agricultura como de transformación desde luego de acuerdo con los municipios y de acuerdo con la diputación foral de bizkaia así lo han llevado a cabo por tanto yo creo que

alusión a mi partido en bizkaia creo que está un poquito fuera de lugar porque no creo que se ha hecho

realizar ningún disparate por aclarar algún concepto la pesca de cerco también es artesanal en este momento en euskadi no existe ninguna pesca que no sea artesanal hay diferentes artes de pesca pero todas ellas artesanales y todas ellas calificadas

tanto en lo que son la pesca de bajura tanto

sea utilizando unas artes u otras pero también en los de altura y en los atuneros congeladores están calificados como realmente sostenibles y no ponga caras extrañas porque así lo son y así lo son son los pesqueros los buques

vamos a decir las cosas como son y no vamos a inventarnos conceptos extraños hablaba usted de las descargas de pelágicos que fueron en ondarroa por cierto y bueno yo creo lo que tenemos que trabajar es por continuar dando cauce a la industria trasformadora es cierto

no tanto que se plantan y cómo sino cómo se transforma esa es la competencia del gobierno vasco en cuanto a desarrollo forestal y así lo hemos hecho y así

hablado y que hay que considerar que si vamos a cambiar el tipo de foresta que vamos a tener el tipo de bosque también habrá que adaptar la industria y tendremos que trabajar con ellos para que así sea

en este momento estamos inmersos en un desarrollo de adaptación de ese tipo de industria y en segundo lugar precisamente

es donde más industria conservera tenemos una industria conservera de calidad y que también

otra actuación que estamos llevando a cabo con el departamento de turismo comercio y consumo para que en estos momentos lo que es bonito del norte sea calificado como tal

otro tipo de variedades que no son bonito del norte y sin embargo son etiquetadas como tales por ejemplo luego son actuaciones complejas que hay que además abordar desde el punto de vista de la unión europea de cómo se llevan a cabo y es nuestra máxima prioridad

de primerísimo nivel pero no solamente eso también en existen productores de txakoli por ejemplo luego con todos ellos tenemos que trabajar para tener unas empresas realmente productivas y esa va a ser nuestra línea de actuación una vez de que se haya recuperado o se haya revisado perdón

recuperaremos algunas actuaciones que son importantes también desde el punto de vista de infraestructura ferroviaria

y es una salida por carretera de su infraestructura portuaria que realmente responda a las necesidades

que responda a una infraestructura que estamos modernizando y que vamos a tener modernizada en el puerto

muelles que nos permitan dar el mejor servicio a nuestro sector pesquero beraz nik uste dut borondatea hori dela demostratu dugula ekintzekin ez dut atzera begiratuko

sí gracias señora presidenta señora consejera la asociación de bodegas de rioja alavesa abra decidió en una asamblea

esta decisión desde nuestro punto de vista como grupo popular se ha tomado

al no haber sido informados las ciento nueve bodegas asociadas de los

del nombre de la asociación y cambiarlo por euskadi así como incorporar a la asociación bodegas de otras denominaciones de origen

solo un diez por ciento de las bodegas asociadas apoyaron estos cambios

estaba su departamento informado de estos cambios estaba informado su departamento de las conversaciones de abra con las denominaciones de origen txakoli y de sidra ha mantenido señora consejera su departamento conversaciones sobre este asunto con abra y con las denominaciones de origen txakoli y sidra

de apoyo económico por parte de las instituciones en los presupuestos

salvo en algún año de crisis muy excepcionalmente pero me gustaría saber también si su departamento realiza otro tipo de aportaciones a lo largo del año a abra a parte de la que específicamente

eskerrik asko presidente anderea señora lópez de ocariz en primer lugar

que decir que el cambio de nombre al que usted hacía referencia desde luego obedece a una decisión absolutamente privada de una serie

respetable sin embargo sí quiero aclarar y quiero dejar constancia de que este gobierno vasco no tenía

al respecto hasta que se enteró por la prensa probablemente igual que usted es más hace escasamente un mes mantuvimos la última reunión con la nueva dirección

la presidencia y con la dirección donde se abordó otro tema relacionado con los vinos de rioja alavesa en ningún momento se puso sobre la mesa

no solamente no estamos informados si no que nos informamos por la prensa sin embargo en un mundo globalizado desde luego somos conscientes de que la estandarización nos hace perder valor

vitivinícola especial específica típica y con una calidad de sus vinos como la de rioja alavesa ha de ser cuidada y ha de ser trabajada

sin perder las características de rioja alavesa por tanto una decisión privada sí de la que el gobierno no tenía constancia y que consideramos que rioja alavesa debido a la calidad de sus vinos tiene que continuar haciendo referencia a esa especificidad y a esa calidad de esos vinos eskerrik asko

una marca única reconocida mundialmente que ha iniciado un camino importante para coger una reivindicación de rioja alavesa

por lo tanto entendemos que tenemos un valor y un potencial casi

de origen txakoli realizan y también pedimos que se les atienda en su mayor demanda si es que eso o requieren de ese apoyo también a la asociación de bodegas de rioja alavesa pero insistimos una vez más que

y que la representación de la diputación de álava en el consejo es necesaria para defender los intereses de los viticultores riojano alaveses cuando se tratan temas de su competencia que sea el gobierno vasco quien

y se aprobó en esta cámara en dos mil diez en aplicación decía su iniciativa en aplicación del principio de subsidiaridad y en el marco competencial transfiera o comparta la representación de la comunidad autónoma vasca en el consejo regulador denominación rioja a la diputación foral de álava algo muy sensato que se apoyó

porque creo que eso también ayudaría a tener una realidad más ajustada o ser más ajustado a la realidad y competencia que en este momento ostenta cada institución

forzaron la celebración de una asamblea extraordinaria para tratar de manera monográfica este asunto sin embargo visto

de bodegas de euskadi abe no se da por enterada del malestar de sus socios

creemos que desde el gobierno vasco se debe poner orden en estas aventuras auspiciadas por unos pocos que tienen repercusión

y además utilizar nombres de otras denominaciones de origen sin autorización de estas ni interés manifiesto por lo tanto señora consejera aquí sí que tiene que poner orden

lo tapamos con vinos de euskadi esto es sorprendente llamativo y nos preocupa nos preocupa mucho
se ha hecho mucho trabajo y hay que defender esta denominación eskerrik asko lópez de ocariz andrea denbora amaitu zaizu

entendemos y compartimos su preocupación señora lópez de ocariz porque creemos que prescindir de la marca rioja alavesa por parte de esta asociación de bodegas desde luego

no la compartimos nos corresponde respetarla pero no la compartimos es más creemos que rioja alavesa tiene la entidad suficiente para que trabajemos para que sea conocida y reconocida además

a todo un sector que realmente está creciendo en el ámbito tenemos que potenciarlo más que esconderlo tiene personalidad y referencialidad propia para continuar siendo así

aunar para trabajar dentro de una asociación diferente por supuesto trabajaremos con ellos y lo haremos pero tiene que nacer de la voluntad conjunta de todos ellos es decir sí

más la sidra más abra por ejemplo o la asociación de bodegueros correspondiente quieren tener una asociación unificada para

nacer de la voluntad conjunta de todos y cada uno de ellos entendemos que no puede ser fruto de la voluntad de una parte que pretenda asumir la voluntad del todo desde luego no entendemos que se pueda por ninguno de ellos renunciar a su propia denominación de origen porque es un valor en sí mismo

estamos haciendo un trabajo muy relevante de cara a ser conocidos internacionalmente y a posicionar nuestros vinos internacionalmente que es donde realmente puede existir un mercado para crecer desde ese punto de vista vamos a trabajar con todos y cada uno de ellos pero tratando de llegar a ese acuerdo que entendemos que tiene que ser importante y como usted decía ayer se produjo una asamblea que creo que fue relevante que va a forzar la convocatoria de una nueva asamblea

el hecho es que va a existir otra asamblea que entendemos que puede mejorar la situación y que puede clarificar un poco algunas de las decisiones ya adoptadas

diferenciación buscando su posicionamiento y trabajando de forma conjunta con el sector pero uno de ellos no puede ni buscar la referencialidad única para todos ni hacerse cargo de la representación de todos y cada uno de los sectores vitivinícolas

buenos días señor consejero las directrices de ordenación del territorio que ha aprobado su departamento provisionalmente en noviembre de dos mil dieciocho recogen unos objetivos para el hábitat urbano los tengo aquí

superar los desequilibrios sociales y urbanísticos aprovechar el espacio urbanizado garantizar el disfrute del patrimonio histórico y cultural para la ciudadanía y garantizar una dotación de servicios públicos que faciliten la socialización en donostia en san sebastián estos principios están siendo flagrantemente por los planes urbanísticos del ayuntamiento de ahí que la ciudadanía haya decidido incluso y esto es sorprendente echarse a las calles mañana para denunciar esta situación y yo le quiero preguntar dentro de sus competencias las competencias de su departamento

usando todos los instrumentos jurídicos que dispone para ello gracias eskerrik asko becerra jauna

gracias señora presidenta señor becerra usted sabe que mi disposición es siempre la de contestar puntual y cumplidamente

y para eso me gusta recabar la máxima información disponible sobre lo que se me pregunta pero a veces no me lo pone usted fácil

a qué se refería concretamente y no he llegado más que a sospechar

me pregunta si nuestro departamento tiene intención de cumplir y hacer cumplir

a varias modificaciones del plan general de ordenación urbana que irían en su opinión

no sé a qué modificaciones del plan general de organización urbana se refiere en concreto

seis en los últimos dos años sobre muy variados ámbitos y hay dos más que se encuentran pendientes de informe de la comisión de ordenación del territorio

las directrices vigentes o la revisión

en proceso que sabe usted que se han aprobado provisionalmente pero que entraran en vigor cuando se aprueben definitivamente

según establece la ley de ordenación del territorio del país vasco de mil novecientos noventa y la ley del suelo y urbanismo de dos mil ocho que sin duda conoce

del territorio del país vasco que debe pronunciarse sobre su adecuación

y sectorial en consecuencia la intención de nuestro departamento y lo que hace de hecho la comisión de ordenación del territorio es cumplir con las obligaciones legales

ha visto bien por dónde iba y ha respondido correctamente efectivamente han tramitado seis planes urbanísticos más dos ocho deberían haber modificado todo el plan general de ordenación urbana y no lo han hecho primer incumplimiento del ayuntamiento de donostia san sebastián pero es que todos esos planes urbanísticos que están promoviendo

impulsar una especulación urbanística salvaje a la que ustedes cuando han tramitado los anteriores planes no le han puesto coto por ejemplo cuando se habla de mejorar la calidad de vida de los residentes el ayuntamiento de donosti no respeta las zonas verdes incluso incluso las laderas y barrancos como zonas verdes para acreditar que ya tiene el mínimo que establecen las normativas

el ayuntamiento de donosti se mete en las zonas no urbanizables como por ejemplo

para recalificar cuatro hectáreas de terreno para hacer

también el ayuntamiento de donostia san sebastián incumple la ley del suelo en cuanto a viviendas de protección oficial porque

los requisitos de la ley del suelo y por lo tanto la dirección de vivienda ha ido callando durante estos tiempos a pesar de que el plan municipal de vivienda del ayuntamiento de donostia san sebastián

de vivienda protegida y sin embargo de cara al dos mil veinticinco como mucho se plantean hacer mil novecientos viviendas ustedes callan y otorgan también

el ayuntamiento de donostia san sebastián actúa contra el comercio local aprobando planes de grandes superficies comerciales como el plan belartzamenos dos más de doscientos mil metros cuadrados de suelo industrial

y donde cuando ellos han incumplido la normativa de vertido de residuos la viceconsejería de medio ambiente de su departamento también ha callado y ha otorgado

ha intentado derribar el palacio de bellas artes de mil novecientos catorce ha intentado cargase los viveros de ulía el pabellón oasa que es de arquitectura bauhaus la iglesia de san bartolomé han llegado a derribar y eso le supuso una multa de mil quinientos euros una iglesia neogótica

solo han mantenido las fachadas y así todo donostia es a día de hoy una ciudad de fachada bonita por fuera

tanto el partido nacionalista vasco como el partido socialista que están en el gobierno

le agradecería que en lo sucesivo en la medida de lo posible

más o menos en concreto para conseguir también respuestas más o menos en concreto yo lo que le puedo decir es una cosa la comisión de ordenación del territorio aplica la legalidad se pronuncia en sus informes sobre la adecuación de las modificaciones

en su formación conjunta con respecto a las dot y también a los planeamientos territoriales y sectoriales eso es así de claro y así de crudo y de conciso

la comisión de ordenación del territorio no se casan con nadie

porque se basan como le decía en el cumplimiento estricto de la legalidad

no son las directrices que no están vigentes a día de hoy aunque estén aprobadas provisionalmente y que pretendemos que entren en vigor cuando se aprueben definitivamente

incluso siendo vigentes las modificaciones de planeamiento que se hayan aprobado inicialmente antes de la aprobación definitiva de las directrices de ordenación del territorio a esas no les podrán ser de aplicación

en ese sentido yo insisto no creo que tiene que haber ninguna duda en cuanto a lo que es el cumplimiento y el velar por la legalidad que hace la comisión de ordenación del territorio en la que no solamente está mi departamento sino está un conjunto de departamentos del gobierno que velan por el cumplimiento

presidenta consejera consejero señorías

cinco de marzo el boletín oficial del país vasco publicó el decreto veintinueve barra dos mil diecinueve que regula los servicios de en las residencias para mayores es decir servicios de farmacia depósitos ubicados en esas residencias de la comunidad autónoma vasca

mayores pequeñas públicas privadas en cualquier caso se abordaba esa cuestión de los servicios de farmacia

crítica de los colegios oficiales de farmacéuticos vascos esa reacción crítica que han tenido en relación con el mencionado decreto y por eso

que ha suscitado esa reacción crítica porque vimos que el pasado doce de marzo

oficiales de farmacéuticos se empleaban a fondo en poner sobre la mesa lo que ellos llamaban muchas dudas ambigüedades del decreto incógnitas en la redacción de esa norma de ese decreto y especialmente

decían los responsables colegiales que el decreto no va a ser mejor que la regulación se mantiene que podía ser redactado en otros términos es decir que genera

socioeconómicos y de personal cuestiones que son muy llamativas en relación con lo que tiene que abordar ese decreto que se ha publicado por eso queremos conocer la opinión de su departamento sobre esta situación es decir es difícil

como este si no se hace de la mano de las organizaciones colegiales farmacéuticas que son que ya lo hemos visto muy activas y sobre todo y el elemento fundamental

por eso sí que queremos que nos hable por qué estamos en esta situación actualmente gracias eskerrik asko barrio jauna

sailburua barrio jauna el decreto veintinueve barra dos mil diecinueve tiene por objeto regular los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores en euskadi y le diré que es también

en concreto el compromiso ochenta y dos atención farmacéutica en su iniciativa número dos recoge la necesidad de una adecuada atención farmacéutica a todas las personas atendidas en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios de euskadi públicos y privados le diré

supone además una adecuación normativa y da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo veintisiete punto cuatro de la ley

farmacéutica del país vasco y el artículo seis del real decreto ley dieciséis barra dos mil doce de veinte de abril de medidas

garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud que fue aprobado en madrid por ustedes beraz dekretu honekin

por parte de las organizaciones colegiales de farmacéuticos en relación con la redacción de este

el servicio de depósitos y de farmacia en las residencias

hasta qué punto no les gusta además es decir vuelvo a decir la colaboración de colegios profesionales de farmacia fundamentalmente siempre ha sido

preocupante desde nuestro punto de vista que también puede afectar a esa labor de la asistencia de calidad a la que usted se refería hasta qué punto no les gusta el decreto que están hablando de la presentación

en informaciones especializadas y nos llama la atención el hecho de que desde ese doce de marzo donde hicieron esas menciones o esa crítica

esa discrepancia con el decreto no se habían dado pasos para clarificar esa situación y despejar las dudas y esas incógnitas no lo hemos visto por eso es esta pregunta que le

entendemos que sí que hay cuestiones que despejar en relación con esas críticas que ha hecho el colegio y me gustaría que usted me respondiese que contestase a través de esta interpelación a esas críticas se han reunido se ha reunido usted con los representantes de los colegios con las organizaciones colegiales y qué les ha trasladado yo creo que eso es importante que usted misma hable porque vuelvo a decir la situación está ahí es decir

no parece que haya estímulos un debate constructivo que usted
propicie y lógicamente serán compromisos del gobierno pero los compromisos del gobierno hay que cumplirlos eskerrik asko barrio jauna murga anderea zurea da hitza

y la eficiencia de la atención farmacéutica que reciben personas en residencias no tiene ningún ánimo de perjudicar a las farmacias no lo tiene lo único que pretende es adecuar la prestación farmacéutica

en el departamento de salud pero también las diputaciones forales y los propios colegios oficiales de farmacéuticos para desarrollar la normativa en este ámbito además le recordaré que en este decreto se ha contado con las oficinas de farmacia como un agente más de nuestro sistema sanitario

en el decreto vasco se les da la oportunidad de realizar atención farmacéutica a las residencias para personas mayores tanto públicas como privadas de más de cien camas respecto a las dudas sobre posibles ahorros o cómo se ha realizado le diré que el decreto ha incorporado

que analiza la vertiente económica de la prestación farmacéutica en las residencias con detalle rigor y prudencia y también la repercusión que puede tener

en la atención de nuestros pacientes y puede usted consultarlo

consejera compañeros y compañeras egun on guztioi

de estudiar y conocer dos documentos dos importantes documentos del departamento de salud la encuesta de salud dos mil dieciocho

y un documento del ayuntamiento de bilbao la salud de bilbao en cifras

donde explican con mucho detalle las desigualdades en salud por motivos sociales en la población de bilbao y en la población vasca

por eso preguntamos si este conocimiento de las diferencias de salud entre nuestra población está implicando por parte del departamento de salud y por parte de la dirección general de osakidetza planes específicos

planes específicos y presupuestos específicos en cada dirección de la osi
en cada área territorial eskerrik asko

es importante impulsar políticas transversales desde el conjunto de los departamentos del gobierno vasco y también desde el resto de instituciones públicas ayuntamientos diputaciones forales y es lo que estamos haciendo

el gobierno vasco basándose en la estrategia diseñada en el plan de salud dos mil trece dos mil veinte apuesta por integrar la salud en todas sus políticas y es más

quien preside y dirige el comité director del plan de salud vasco

a las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida de los vascos y las vascas

y me estoy refiriendo a nuestro sistema educativo a las políticas medioambientales que desarrollamos a programas para personas mayores como euskadi lagunkoia

a las políticas de vivienda a las políticas de empleo que impulsamos etcétera el gobierno vasco invierte tres cada cuatro euros de sus presupuestos en

destinadas a una mejor calidad de vida de todas las personas además señor uria compartirá conmigo que las desigualdades no se reducen medicalizando a la población hay que prevenir las desigualdades en salud hay que combatirlas desde la prevención y la educación principalmente pero no solo con intervenciones sanitarias aunque sí es cierto que también intervienen en los resultados en salud de la población

debemos trabajarlo desde el ámbito sanitario sí pero también desde el conjunto de las políticas de gobierno eskerrik asko eskerrik asko

coincidir en los discursos es un tema sencillo pero no me ha contestado a la pregunta hay planes específicos en cada dirección de cada osi y en el departamento de salud

en nuestra sociedad en la población vasca existen desigualdades sociales que manifiestan desigualdades en salud ostensibles

pero son también hechos sociales pues no todas las personas son afectadas de la misma manera teniendo cuerpos iguales por ejemplo

una mujer negra inmigrante que vive en el barrio bilbaíno de san francisco que no tenga estudios primarios y que trabaje en el sector de los cuidados o en el comercio

que una mujer blanca que viva en indautxu que tenga estudios superiores y que trabaje en la enseñanza el denominado gradiente social de la esperanza de vida también se manifiesta

en distintas paradas del metro del metro de bilbao observando gradientes de tres cuatro y hasta cinco años de diferencia entre distintas localidades en la misma trayectoria la enfermedad y la muerte son hechos que están condicionados por determinantes sociales

el acceso a servicios sanitarios de calidad la educación la cultura el entorno urbano son parte de esos componentes

un indicador que llamamos índice de privación el índice de privación es un valor sintético que se aproxima a las condiciones de vida

de privación por distritos postales conocemos las tasas de muerte por distritos postales conocemos las enfermedades por distritos

por qué no el departamento de salud asume un liderazgo mayor en el gobierno vasco como bien ha dicho la consejera y por qué no las direcciones generales y las direcciones específicas de las

tienen planes específicos y presupuestos específicos para abordar por una parte social pero por otra parte la calidad de los servicios sanitarias e inversiones de recursos desiguales porque de lo que se trata

es favorecer la desigualdad nosotros la única pregunta que queremos decir es si el liderazgo del departamento de salud

tienen que ver con planes específicos para corregir desigualdades que ya

eta euskal gizartearen osasun emaitzak onak dira le puedo poner un sinfín de ejemplos de planes de actuaciones concretas que venimos desarrollando desde el departamento de salud y osakidetza para evitar desigualdades y poner el foco sobre todo en aquellas personas

o que precisan mayor atención el padi la estrategia sano de prevención de la obesidad infantil el plan de adicciones el programa menores y alcohol las redes locales de salud

la propia estrategia de fortalecimiento de atención primaria que tenemos en el momento actual en marcha los nuevos profesionales van a ir encaminados a aquellas áreas con mayores necesidades sanitarias y podría seguir

pero le vuelvo a repetir que para abordar las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida del conjunto de las personas este gobierno actúa de una manera transversal

que inciden directamente en la reducción de la desigualdad y a favor de una mayor equidad me refiero a las actuaciones de género

a las ayudas del copago farmacéutico a la coordinación existente entre la red de salud mental y los pisos tutelados a la importante coordinación socio sanitaria

gracias señora presidenta buenos días a todos señora consejera casi novecientos personas asesinadas por eta tres mil quinientos atentados trescientos siete de ellos sin resolver

casi cinco mil actos de kale borroka de los muertos en torno a quinientos eran miembros

el resto políticos periodistas jueces empresarios gente que pasaba por allí

y uno más del cuerpo de miñones fueron asesinados por eta la policía vasca uno de los símbolos de nuestro autogobierno sufrió veintisiete atentados de eta entre mil novecientos noventa y dos mil once

la macabra media mostraba cómo los ertzainas afrontaban un ataque de la banda terrorista o de su entorno cada

incidencias cada dos días entre estos actos de kale borroka tenemos por ejemplo actos como el que se intentó quemar vivos

y algunos de ellos sufrieron las secuelas que sufrieron y que hoy en día siguen padeciendo también la policía local en euskadi sufrió en sus filas el zarpazo de eta aumentando así la cifra de asesinados entre

voy a citar una frase que no es mía abro comillas

el hostigamiento de eta y de todo su entorno estas palabras no son mías pero le sonará señora consejera porque son suyas pero a pesar de esto

o que si no se olvida se distorsiona porque este gobierno su gobierno ha intentado cambiar la historia de eta plantearla de una manera que nada tiene que ver con lo que sucedió

así por ejemplo pretendían inculcar la teoría del conflicto a alumnos vascos entre quince y dieciocho años

para que estudiaran en el último trimestre de este curso la historia reciente de euskadi y los efectos del terrorismo a través de un programa herenegun elaborado por el gobierno vasco al margen de lo que este grupo ya puso de manifiesto expertos historiadores e investigadores consideraron que el resultado final no era acertado y así por ejemplo el filósofo y doctor de ciencias políticas martin alonso zarza decía hay una ausencia crucial por qué mataron los terrorista de eta

el relato del pasado no consiste solo en lo que se cuenta sino también en lo que se omite y seguía diciendo que llamaba especialmente la atención en ese documento

a los desterrados o a los escoltas y señalaba que tomaban la palabra las victimas más cercanas a la postura del gobierno vasco y se obviaba a las más combativas otro como el doctor

generaban dos impresiones inmediatas por un lado una difuminación de lo principal una sensación de que no se explica lo ocurrido y por otro una frialdad y falta de empatía bien ya vemos que de cambiar las referencias a eta no es nuevo en su gobierno porque ahora hemos asistido a la noticia que los estudios a los futuros policías la referencia a eta no se da

lo que se ha denunciado y parece que tampoco en el temario para acceder a la academia le pregunto si eso es así

tajante por eso se lo queremos preguntar hoy a través de esta interpelación y sí fuera así no es explicable

ni porque como policías debieran conocer lo que se hizo para luchar contra eta las medidas que se adoptaron porque puede servir de referencia para otros terrorismos que siguen atacando

en la academia a los futuros policías lo que han sufrido y las consecuencias del terrorismo de eta en la sociedad

que no enseñar esto en la academia es una falta absoluta de respeto para con ellos para su lucha contra el terrorismo

mire voy a ser sincera con usted con este parlamento si fuera así si hubiera desaparecido no me sorprendería la decisión tomada

no me sorprendería pero desde luego sí me produciría una profunda tristeza un profundo desencanto comprobar cómo quienes tienen la responsabilidad de este país

con tanto desprecio a las víctimas del terrorismo y a sus propias obligaciones

de dónde ha desaparecido de los dos tanto del temario como de lo que luego se imparte en la academia desde cuándo ha desaparecido

no se les hace ya ninguna referencia a eta cuál es la razón de la desaparición y sí usted me va a decir que no ha desaparecido

cómo aparece en qué contexto se dedica específicamente un capitulo a eta cómo se hacen esas referencias

locales que ahora no tienen esa formación y sin embargo ertzainas y policías locales de promociones anteriores señalan que sí se les instruía sobre eta sobre los asesinatos que se habían cometido

se les contaba qué medidas se tomaban para combatir el terrorismo las medidas que los propios agentes habían tenido que tomar para protegerse las medidas de autoprotección las consecuencias que el terrorismo había tenido se les hablaba del porqué de los trajes ignífugos del porqué de los coches

ahora cuentan los alumnos que se les habla de eta pero siempre de manera extraoficial nunca cuando se imparte clases sino como mucho en la cafetería o a título personal algún profesor es esto correcto porque sí es correcta la decisión de eliminar del temario de arkaute cualquier referencia a eta díganme ustedes

asumen con la deslegitimación del terrorismo qué responsabilidad asumen con esa tarea que tenemos por delante la sociedad en su conjunto para evitar que vuelvan a repetirse los horrores que hemos tenido que sufrir en esta tierra durante tanto tiempo qué responsabilidad asumen para transmitir a las nuevas generaciones de agentes lo que hicieron

al terrorismo de eta para combatirlo qué responsabilidad asumen

lo que se ha denunciado desde luego parece que ninguna parece que se opta por mirar para otro lado por pasar página por no llamar a las cosas por su nombre y me produciría como le decía una gran tristeza y desazón comprobar cómo pasan por encima de la memoria de los ertzainas y de los policías locales que fueron asesinados por eta qué propósito tienen

por qué parece como se ha denunciado que tiene contenido la guerra civil la represión franquista el estatuto pero no eta

a nuestra convivencia democrática cómo se puede pasar por alto lo que todos sufrimos

es que les parece un tema menor algo irrelevante que hayamos padecido la imposición del miedo a las pistolas durante cuarenta años

quedan trescientos asesinatos de eta sin resolver entre ellos el de ana arostegui y el de javier

cómo se van a resolver y perseguir si ni tan siquiera

señora llanos con relación a esta interpelación que me presenta el grupo popular me siento en la obligación de recordarle tres cuestiones tres aspectos que a tenor de los argumentos que ha expresado en la propia justificación de la interpelación usted elude quiere eludir

hablar por el tema en primer lugar recordarle que las personas que optan a ser ertzainas y policías locales son mayores de edad son personas

diplomados técnicos muchos con titulación superior personas

con el terrorismo de eta han sido testigos cercanos

testigos directos de las graves consecuencias y además en su currículum escolar han recibido información y formación sobre

pero hoy son testigos también de otras formas de terrorismo de actividad criminal y sobre todo trabajan por las necesidades públicas de

que ya poco tienen que ver con ese tiempo concreto oscuro del terrorismo de eta un tiempo en el que los objetivos de la preservación de la seguridad pública en euskadi interferían radicalmente con los objetivos de la banda terrorista entonces comprenderá usted que era

obligada la formación en tácticas en técnicas para afrontar aquella amenaza que se extendía en todos sus niveles de riesgo sobre la totalidad de la ertzaintza y sobre la sociedad en su conjunto por suerte los ertzainas y las policías locales de estas últimas

han accedido a esta profesión de servidores públicos después de que eta declarara el cese de la actividad armada ahora

en el proceso de incorporación han recibido y están recibiendo otro tipo de formación y se están integrando en una organización

una organización que entre otras muchas medidas ha modificado instrucciones operativas como la instrucción recordarán ustedes

también están recibiendo formación nueva en tácticas y técnicas policiales de autoprotección en técnicas y tácticas policiales para

nuevas formas de criminalidad y de terrorismo por tanto una organización adaptada a las necesidades de seguridad que tenemos hoy en

una segunda cuestión ya no estamos bajo la amenaza específica del terrorismo de eta pero existen otros riesgos

en la que presenté el plan estratégico de la ertzaintza contra el islamismo radical y otras formas de terrorismo internacional un plan que

de la unión europea de lucha contra el terrorismo una estrategia que se apoya en cuatro pilares prevenir proteger perseguir y responder

acumulada y en la que en determinados aspectos ha sido pionera

por postulados de radicalidad y animados a llevar a cabo acciones terroristas esta es la situación en la que las nuevas generaciones

lo que me lleva a subrayar también algo que habría que tener en cuenta una tercera cuestión hoy la ertzaintza no se prepara para hacer frente a eta

lo tuvo que hacer durante muchos años y además de una forma intensa con muchos recursos con mucha dedicación pero eso se ha acabado eta declaró el alto el fuego

y hace un año se disolvió lo que sí persiste es la experiencia policial adquirida en la labor llevada

usted hay investigaciones que están pendientes de resolución y seguirán su curso y siguen su curso y sobre todo porque hay que tratar de mantenerse siempre

cualquier amenaza que ponga en peligro la paz y la convivencia en euskadi

policial acumulada también persisten vivencias de dolor vivencias de sufrimiento y heridas que como usted sabe todavía sangran en el

y de quienes siguen luchando contra esas secuelas físicas y psicológicas de actos vandálicos de actos de terror

en extremo cuando no han hipotecado incluso su vida personal y profesional por eso le animo a releer el informe sobre injusticia

y sus familiares a consecuencia de la amenaza de eta entre mil novecientos noventa y dos mil once un informe elaborado por un equipo de instituto de derechos humanos pedro arrupe de la universidad

por encargo de la secretaria general de paz y convivencia a partir de ahí señora llanos sinceramente

en los procesos de selección que hoy están accediendo a las nuevas plazas de agentes de la escala básica de la ertzaintza qué hay de malo en que

para combatir desde la policía vasca otros riesgos de radicalización de terrorismo o

que intentan minar el bienestar y el progreso de euskadi

una parte importante de los planes de formación de la academia imparte presenta cada año como digo en el consejo rector consejo rector en el que están presentes además del departamento y la propia academia sindicatos

participaron en su momento también miembros del partido al que usted representa representando a instituciones como la diputación foral de álava el ayuntamiento de gasteiz planes y programas de formación tanto para aspirantes a ertzainas y policías locales como cursos de actualización

de la policía que está en activo por tanto

ni al gobierno sobre realidades que no quiere reconocer por ejemplo que los agentes de protección ciudadana

de atentados de carácter terrorista a día de hoy

y más de cuatrocientos cincuenta agentes de las policías locales han pasado por estos cursos por los cursos también

derivado precisamente de ese plan estratégico contra el terrorismo

desde dos mil diecisiete o reconocer también que con cierta

como el que se realizó recientemente aquí en gasteiz en enero

comercial es evidente que existen nuevas amenazas es evidente que nuestra seguridad requiere adoptar procedimientos nuevos

está ahí forma parte del conocimiento policial es evidente

vividas que todo lo aprendido sirve y está sirviendo para esta nueva formación para abordar estos nuevos riesgos estas nuevas amenazas de la seguridad confundir eso y tratar de decir que se quiere ocultar el pasado de
eta son dos cosas bien diferentes eskerrik asko eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta señora consejera cuanto circunloquio

a lo que le he preguntado que es bien sencillo bien sencillo que es aparece o no aparece

del temario si aparece cómo aparece como aparecía antes o de forma distinta si no aparece desde cuándo no aparece

dos cuestiones son bien distintas una cosa es que eta ya no exista y otra cosa es que eta no haya existido nunca que son dos cosas

de toda la formación que se da en la academia que ya me imagino que será mucha

de terrorismo pero precisamente porque hay nuevas formas de terrorismo no se puede hablar claramente del terrorismo de eta de lo que se sufría en aquellos momentos con el terrorismo de eta de lo que se hacía para combatir ese terrorismo de las medidas que se tenían que adoptar en ese momento porque pueden servir

pero qué experiencia acumulada si no se habla si no se menciona a eta y usted viene a decir que es que ahora acceden a la academia son diplomados técnicos que han convivido

con eta y que saben lo que era eta no no y desgraciadamente los que accedían antes también también sabían perfectamente

y convivían con el terror diario de eta como le digo

pero efectivamente eta ha existido y eta ha causado mucho daño a este país y lo que no se puede pretender es hacer desaparecer a eta no hablar

como bien ha dicho hay delitos todavía sin resolver que se tienen que perseguir a los alumnos de arkaute cómo van a

después cuando sean agentes una investigación contra una organización que ya como no existe como no existe

en qué momento en qué capítulo y cómo se hace referencia y yo les hablaba antes de opciones y tristemente tengo que señalarle señora consejera que ustedes están optando por el camino que en tantas y tantas ocasiones el nacionalismo seguía

en el que han pesado más o pesan más cálculos políticos intereses de partido y estos vuelven a estar por encima de lo que les corresponde como gobernantes como responsable de las instituciones que es por encima de todo la deslegitimación del terrorismo miren eta fue derrotada por la sociedad vasca por el conjunto de los ciudadanos vascos que supieron plantarle

y con esa obviando como hacen al terrorismo de eta porque no nos ha dicho en qué

ustedes están despreciando el tesón y la valentía democrática de esos vascos que lucharon contra eta se está haciendo el caldo gordo hoy se encargan y pretenden blanquear a eta a quienes se sientan en este parlamento precisamente con ese mandato con el mandato de blanquear esa trayectoria

eta ya no existe como organización terrorista pero el coste ha sido muy alto muy doloroso sus consecuencias siguen estando ahí siguen estando en la ertzaintza en los familiares de los asesinados en los familiares

sin resolver y tenemos la obligación de señalar las responsabilidades de esos sufrimientos de trasladas a las generaciones futuras de vascos que eta fue una organización

delante la vida de muchas personas y nosotros no vamos a renunciar a esa obligación aunque es evidente que algunos sí porque está claro que les incomoda y que lo que queda claro es que no se va a contribuir a dar testimonio de lo injusto y lo injustificable que fue el terrorismo de eta porque

no se asume esa obligación y vuelven la cara para otro lado no me sorprende esta falta de determinación pero sí me entristece porque ponen en evidencia una vez más su falta de claridad

la quieran borrar ustedes o no la página existe y espero

llanos decepción y tristeza es lo que me produce su intervención aquí tratando tratando no acusando a este gobierno de tratar de deslegitimar el terrorismo de eta acusando de blanquear la acción terrorista de eta cuando usted conoce

todo el compromiso que ha adquirido este gobierno precisamente por ese derecho a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas me produce verdaderamente tristeza tener que volver a este tipo de debates

formemos especialistas en eta porque busque y rebusque en los múltiples procesos de selección de la ertzaintza de policías locales

que no va a encontrar nunca una materia específica que diga y acote la historia de eta como tal insisto estamos en un tiempo nuevo

responde a este tiempo nuevo a este tiempo de renovación generacional a un tiempo en el que las estructuras y la formación las tácticas operativas

tienen que ser nuevas porque así lo exigen las necesidades de seguridad que afrontamos y los servicios que ofrecemos hoy en el día a día y porque así lo exigen también determinados riesgos de terrorismo y crimen organizado presentes y emergentes en un mundo sin fronteras

a repetirlo la experiencia adquirida para tratar de erradicar el terrorismo de eta fue en su conjunto el que impera en la

importante un valor importante e imprescindible en su inteligencia y en su saber hacer policial también porque hay investigaciones como usted le decía en las que la ertzaintza es competente y siguen abiertas para el esclarecimiento de esos crímenes que

investigaciones que siguen abiertas que se sigue trabajando y que siguen formándose para ahondar en esas investigaciones pero junto a estas

eta la que sigue viva viva con fuerza en la en la academia vasca de policía y emergencias y también en el departamento de seguridad en gran medida y así lo quiero reconocer desde este

viene realizando labor encomiable que viene realizando la asociación de ertzainas y familiares víctimas de terrorismo aserfavite

que el primer domingo de junio de cada año fuera el día de recuerdo el día de reconocimiento

corresponde celebrarlo en arkaute y como todos los años participarán también familiares allegados de las víctimas y también en esta ocasión como en otras ocasiones

el lehendakari pero en esta ocasión el acto además tendrá un contenido nuevo lo vamos a celebrar de una manera especial tal y como anunció el año pasado el lehendakari

de junio inauguraremos un espacio permanente de recuerdo

en el museo de policía vasca en arkaute un espacio de recuerdo y homenaje permanente que trate

del movimiento de resistencia hemen gaude un movimiento de resistencia

el acoso y el terrorismo de eta y el espíritu del pebetero que simbólica el recuerdo y el homenaje a todos y a todas las ertzainas víctimas de un terrorismo implacable

y cuya solución parecía un sueño imposible de cumplir pero que finalmente se cumplió eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea
gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa javier ruiz de arbulo

señoras consejeras señorías buenos días a todos la flota de vehículos de la ertzaintza se ha sustituido de manera satisfactoria

la respuesta a la pregunta que le formulé en noviembre señora beltrán de heredia sobre qué estaba pasando

por los nuevos patrulleros que ha comprado el departamento en un contrato multimillónario yo no sé qué le produce satisfacción a la señora consejera ni sé si esa satisfacción que nos trasladaba desde la tribuna

y si hoy sigue contenta con esa actuación nosotros le apoyamos en la renovación

es un gasto muy importante usted ha comprometido un gasto muy importante de este gobierno en una necesidad que tenía nuestra

pusimos una enmienda para que se renovaran también la flota de los vehículos del cuerpo de miñones y usted lo ha llevado a cabo de manera correcta

en contacto con nosotros y nos habían dicho que efectivamente esos vehículos no eran los más adecuados y usted me dijo que sí insistió de manera satisfactoria se ha producido la renovación nos dijo

me alegro nos dijo que tenían los certificados necesarios de industria porque se habían llevado a cabo modificaciones sobre el soporte básico o comercial que se vende a todos los ciudadanos

nos dijo que cumplían todas y cada una de las prescripciones técnicas del contrato también nos alegramos eso está bien pero no nos dijo que esas prescripciones técnicas igual no eran las más adecuadas y cuando yo le pregunté es que hay agentes que se quejan me dijo usted sí tenemos unas veinte quejas

esas quejas eran fotocopias de un determinado sindicato y yo lo achaque a ese enfrentamiento esa pequeña guerra que mantiene usted con los representantes de los agentes de la ertzaintza en el tiempo ya un enfrentamiento antiguo y dije bueno pues habrá habido algún problema y esto es una jugarreta de un sindicato bien ahí me quede y a mí convenció señora consejera a mí me convenció dije pues vale pues será cierto

que por lo visto a usted no le habían dado toda la información porque yo dudo mucho señora beltrán de heredia que usted suba a la tribuna y no nos diga la verdad

a mí me puede engañar pero cuando usted responde a un parlamentario en esta cámara está respondiendo a toda la cámara no a una pregunta individual está respondiendo a la sociedad

no nos dijo seguramente porque no le habían informado que un mes antes había contratado ya a dedo un contrato menor un informe

y es curioso tenía veinte quejas fotocopiadas de un sindicato

pero no nos dijo que a parte de esas quejas otro sindicato el mayoritario

el mayoritario había acudido a la inspección de trabajo de su vecina de escaño y que la inspección de trabajo posteriormente le ha dado un buen tirón de orejas

primero fue el informe sobre la economía de los vehículos contratado a un doctor a un experto en medicina laboral en salud laboral

el que ya decía que esos vehículos tenían cosas que eran bastante mejorables la respuesta del departamento básicamente ha sido que cada x tiempo cree que es cada hora hagan ejercicio de veinte minutos de estiramiento toma ya

porqué necesitan hacer estiramiento los agentes

por qué tiene usted que contratar un informe de un ergónomo porque ya sabía entonces

y que la inspección de trabajo le iba a echar en cara que había dos

sobre los derechos de los trabajadores el primero porque no se contó en su momento con los representantes de salud laboral a la hora de modificar las condiciones del puesto de trabajo como son la compra de los vehículos no se les consultó y la ley de prevención de riesgos laborales del noventa y cinco le obliga a ello y se lo ha tenido que recordar el departamento y le ha pedido que

lo hagan que cuenten con esos delegados de riesgos laborales de salud laboral

es que hay que hacer bastantes cambios en los vehículos de la misma manera que recoge las opiniones del ergónomo que usted contrató que si cambiar los asientos de coches qué caray si están tan bien porqué hay que cambiarle los asientos a los coches que si hay que

del espacio que ocupan los agentes caray pues no tiene mucho sentido si están tan bien por qué hay que recortar esa mampara que si hay que cambiar la chapa que separa el portaequipajes porque impide la visibilidad interior no se pueden utilizar los retrovisores

hacen esas recomendaciones los profesionales los que saben del asunto

yo no entiendo por qué el departamento compromete casi

y luego resulta que son peligrosos para la salud de los trabajadores lo dice la inspección de trabajo en el informe provisional

le pregunte yo en noviembre que estaban trabajando en ese asunto nos hubiéramos ahorrado tener que interpelarle hoy yo no sé si el informe es definitivo o no es definitivo si se ha

que hay que hacer cambios hay que hacer cambios a la hora de

ordenar el trabajo para que los agentes más altos o más voluminosos vamos a decirlo finamente los que tienen un perímetro

cambien a los vehículos más grandes es que es curioso porque son miles los agentes

pasan por estos coches dos agentes trescientos coches dos agentes al día en cada turno más todos los turnos más la suplencia en un mes son miles de agentes los que se montan en estos coches solo

en la próxima convocatoria señora consejera señora beltrán de heredia en la próxima convocatoria que va a realizar para la academia de

o los que son un poco más grandes o un poco más rellenitos como yo tienen que utilizar los vehículos viejos esa es la solución que han dado desde la organización

a mí señora consejera no me entra en la cabeza que todas estas cuestiones a usted le produzcan satisfacción y entonces por eso yo le he preguntado

la primera es por qué no se contó con los representantes

delegados de salud laboral a la hora de elegir los vehículos por qué no se hizo

y qué medidas está tomando a cabo desde el departamento para

no supongan un grave riesgo para la salud laboral de los trabajadores muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko beltrán de heredia

voy a responderle con la seriedad que se merece

a pesar de la mofa la ironía o el cinismo que usted ha utilizado aquí minusvalorando el trabajo de muchos profesionales que están detrás de esta contratación

minusvalorando el trabajo también de muchos profesionales como los que han podido elaborar ese estudio ergonómico

repaso a lo que fue la renovación de los vehículos que se ha llevado a cabo

renovamos por el sistema de arrendamientos los seiscientos vehículos sin distintivo una renovación que afectaba al parque móvil que usan para actividades policiales que no requieren con distintivos visibles con ello renovamos prácticamente el cincuenta por ciento de este tipo de vehículos con marcas y modelos estándares de mercado siguiendo esa renovación en dos mil diecisiete iniciamos tres procesos de renovación el primero

el que más urgía con ese contrato se trataba de arrendar ciento cincuenta unidades de coches patrulla con habitáculo para traslado de personas detenidas a los que habitualmente nos referimos como coches vehículos con mampara y otras ciento cincuenta unidades que

aprobado en mayo del diecisiete el segundo proceso de contratación por arrendamiento fue para adquirir setenta furgonetas

y atestados de investigación este segundo proceso de contratación

y el tercer procedimiento de contratación por arrendamiento fue aprobado en consejo de gobierno el ocho de agosto también del diecisiete

estamos hablando por tanto de cuatrocientos setenta vehículos

como usted sabe señor ruiz de arbulo estas licitaciones se publicaron como es preceptivo inmediatamente después de ser aprobadas por el consejo de gobierno se publicaron en el diario oficial de las comunidades europeas en el boletín oficial del país vasco en el boe nadie recurrió esos pliegos de condiciones esos pliegos de contratación y los procesos siguieron hacia delante

reparación ni siquiera tampoco esos sindicatos que luego se han quejado tampoco recurrieron esos pliegos de condiciones y en noviembre como usted ha recordado cuando

en ese proyectos estaban incluidas todas estas partidas en ese momento efectivamente por una enmienda del partido popular se incrementó esa partida en quinientos mil euros para adquirir vehículos para miñones

con esa ampliación efectivamente se pudieron adquirir más vehículos que fueron destinados

de miñones y así se puso en marcha la renovación de vehículos una renovación importante una renovación que era apremiante para la una renovación que nunca es sencilla que tiene su complejidad por el hecho precisamente como usted lo ha recordado de tener que adaptar y condiciones esos vehículos homologados de mercado vehículos estándares los mismos que podemos adquirir cualquiera

pero hay que adaptarlos a las funciones y tareas de uso exclusivamente policial y eso tiene sus exigencias y sus complejidades

y algo que a usted le ha parecido tan extraño que yo le dijera han pasado la itv y están homologadas las transformaciones pues mírelo porque no sucede en todos los cuerpos policiales cuando se realizan las transformaciones de los vehículos en cualquier caso no es fácil conciliar las exigencias de operatividad policial con las condiciones de seguridad física higiénica y ergonómica de los usuarios y usuarias

materia es amplia en ella en esta contratación participaron

agentes técnicos de gestión económica y del área de contratación

los servicios técnicos de mantenimiento y de talleres de la propia

el resultado final de esos cuatrocientos setenta vehículos

positivo y satisfactorio le vuelvo a insistir todas las transformaciones que

el resultado es notable de esos trescientos coches patrullas renovados del modelo

la mitad van sin habitáculo para transporte de personas detenidas la

van con ese habitáculo con la mampara y además la

a día de hoy dispone de otros ciento cuarenta y cuatro coches patrulla de los antiguos

no generaron ningún problema y por tanto se pueden seguir utilizando en aquellos casos más extremos o de necesidad que puedan demandar

el cincuenta por ciento adquiridos recientemente un total de cuatrocientos treinta y cinco furgonetas de ellas setenta

adquiridas en definitiva con esto quiero decirle que en el parque móvil de la ertzaintza hay dos mil trescientos vehículos más o menos

menos de tres años por tanto vehículos en el parque de la

hay para atender todas las necesidades e incluso todas las circunstancias personales y creo que esto la ciudadanía lo aprecia porque lo ve en nuestras calles y es consciente del esfuerzo inversor que se ha realizado y también lo aprecia el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la ertzaintza aunque también hay que reconocer que nos queda un margen de mejora y nos quedan cosas por hacer tenemos que renovar

flota de vehículos y lo que muchos valoramos como positivo pues es verdad que otros no lo valoraron así y los sindicatos

adquisición en concreto de los seat león con mampara de la adquisición de esos ciento cincuenta

y hoy tenemos un requerimiento definitivo de la inspección de trabajo un requerimiento que tiene fecha

y por una parte ese requerimiento nos plantea el compromiso de adoptar medidas preventivas técnicas y organizativas aquellas que resulten procedentes y que sean viables para garantizar

personas detenidas no haya riesgo para la salud ni para la seguridad ni de los conductores ni de las personas que se trasladan establece seis meses

que sean viables que sean factibles y en cualquier caso

en ningún caso dice que estos vehículos supongan un riesgo para la seguridad de los trabajadores o para la seguridad de los usuarios

lógicamente también plantea que se adopten medidas organizativas que son las más fáciles de adoptar y que desde luego responden a lo que es

natural son medidas organizativas que se están adoptando que se están poniendo en marcha que se adoptan en cada una de las comisarías de manera que aquellas personas que como usted ha dicho puedan

pueda resultarles más incómodo el vehículo con mampara adquirido puedan utilizar cualquiera de los otros vehículos que existen en el parque

en cualquier caso como digo es un requerimiento de la inspección de trabajo que plantea

técnicas que sean viables lo estamos analizando lo valoraremos a detalle para ver qué implicaciones conlleva y en ese plazo que nos ha establecido de

de todas las medidas que se plantean o que se puedan adoptar porque nuestro objetivo es que

lo hagan en las mejores condiciones también de confortabilidad eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

me lo pregunta usted por la escuela filosófica

no me estará llamando mentiroso impúdico que es la otra acepción que previene el diccionario de la real academia española soy más socrático más simple mucho más simple

a las que se le ha olvidado contestarme otra vez bueno le queda un turno y yo no pierdo la esperanza de que en la segunda intervención me conteste yo no le he hablado de problemas de seguridad

laboral la ley es de seguridad y salud laboral pero en este caso concreto yo no estoy hablando de accidentes yo estoy hablando de lesiones que puedan tener los agentes que utilizan esos vehículos

hacer modificaciones por qué hay que cambiar los asientos si los asientos están bien por qué hay que recortar las mamparas si las mamparas no estorban

de las escopetas si están bien si todo funciona correctamente por qué hay que retirar las tapas de las guanteras sí no golpean en las rodillas de nadie y hay entra todo el mundo señora consejera ordenó usted el código rojo parece que no me parece que no por qué hay que tomar por qué la inspección de trabajo

les sanciona el departamento si los vehículos son correctos si funcionan perfectamente y si ningún agente de la policía a ver que podemos encontrarnos con un agente de dos metros diez de acuerdo no entra en un coche fácilmente

esos vehículos policiales sin ningún tipo de problema por qué la inspección de trabajo

con apercibimiento sancionador lógicamente como todos los requerimientos que hace la inspección de trabajo por qué no se respetaron los derechos por qué no se llamó a los delegados de salud usted me dice que trajo aquí la partida claro

que nosotros cuando vemos una cantidad económica no sabemos que va a elegir unos coches pequeñitos

ponía el importe y nos contó que era un arrendamiento financiero y nos pareció una idea estupenda si nadie le discute eso

se eligieron trescientos vehículos patrulleros en los que los agentes ponen en riesgo su salud laboral y su movilidad

utilizar con facilidad sus armas sus defensas porque resulta que en el asiento no caben con un chaleco antibalas con un correaje puesto con un cinturón con el soporte de la pistola de la defensa el walki

no están cómodos eso lo dicen los agentes salga usted a la calle y pregunte si es que

no se lo han dicho por qué no se contó con los delegados de salud laboral de los sindicatos a la hora de sacar esa adjudicación o de adjudicar directamente a la empresa a la que se ha hecho por qué no se contó con ellos si la ley lo exige es un problema con los sindicatos

los sindicatos lo paga el departamento y lo pagamos los ciudadanos va a tomar en serio las medidas las recomendaciones que le ha hecho la inspección de trabajo va a tomar las medidas se va a poner en marcha o le tendremos que

mil y pico vehículos de la ertzaintza ya sé que están muy bien que son fantásticos

y que no son unas fotocopias hechas por un sindicato las quejas que le han llegado que es una denuncia de la inspección de trabajo y usted en noviembre no nos lo dijo
no lo sabía o no nos lo quiso contar señora consejera eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señor ruiz de arbulo usted viene aquí y parece que hemos comprado coches pequeñitos pues son coches que están en el mercado y que cualquiera de los que estamos aquí utilizamos

insisto para que quede claro en dos mil dieciocho los primero meses y los primeros meses de dos mil diecinueve hemos renovado más del cincuenta y cuatro por ciento de la flota de vehículos

esa inspección la inspección de trabajo sobre ciento cincuenta que llevan mampara

la experiencia precisamente de los órganos de contratación del departamento y de la propia ertzaintza como le he dicho anteriormente en este tipo de

móvil solvente para ofrecer a la ciudadanía un servicio ágil un servicio adecuado seguridad también responderemos a esos requerimientos de la inspección de trabajo con relación al seat león con mampara en ese plazo de seis meses que nos ha establecido estudiaremos de hecho estamos estudiando ya todas las medidas que como dice la inspección de trabajo sean viables y factibles se estudiará su viabilidad

seguridad y salud laboral también estudiaremos y valoraremos detenidamente la forma de llevar a cabo

ese requerimiento el ejercicio de ese derecho porque lo cierto es que esta es una situación

nunca jamás la compra de vehículos ha ido al comité de prevención sí aquellos materiales que son considerados de protección individual

pero nunca los vehículos antes la compra la adquisición de vehículos

de seguridad y salud laboral pero insisto en que estudiaremos detenidamente todas estas implicaciones valoraremos la forma de aplicar

de trabajo y de todas las maneras conviene contextualizar porque hay que ver cuál es la dimensión del problema como le decía antes estamos hablando

la distancia gas la distancia que hay entre la cintura del conductor o conductora y el embrague y el acelerador o el acelerador es apenas dos centímetros más corta que los

mi dedo esa es la diferencia segundo que el estudio ergonómico que

de trabajo además de catalogar los coches como vehículos de excelencia vehículos de excelencia deja claro que todos los problemas identificados en el seat león se encuentran en el rango de un ligero inconfort

término que hace referencia pues precisamente a esa incomodidad a esa molestia y tercero

que se entiende mejor ese nivel de inconfort en los seat

si tenemos en cuenta que los asientos efectivamente delanteros no se pueden retrasar no se pueden reclinar en toda su extensión y si tenemos en cuenta que entre el personal de protección ciudadana que es susceptible de utilizar estos vehículos concretos hay un cinco por ciento un cinco por ciento apenas

como usted comprenderá con esta situación señor ruiz de arbulo un problema que atendiendo al requerimiento de la inspección de trabajo se puede solventar de una forma fácil como le he dicho antes

aplicando y recurriendo al sentido común en el día a día a la hora de distribuir y asignar los vehículos cuestión que ya se está realizando eskerrik asko

ez ziren protesta bilkura baketsuak bakarrik izan los incidentes que se produjeron ese trece

electoral con motivo del mitin de vox fueron por desgracia algo más que actos pacíficos de protesta como

nos consta que entre las personas que allí se concentraron hubo muchísimas personas muchas personas que fueron a protestar y que protestaron pacíficamente pero también es cierto y es real que otras lo impidieron que esto fuera así porque lo cierto es que que actuó violentamente que causó desórdenes públicos

puso en peligro la seguridad de las personas que acudían al mitin y a otros actos que se iban a celebrar en el euskalduna

a agredir a uno de los asistentes a ese acto electoral que agredió

garantizar el normal desarrollo de los actos en torno al euskalduna en ese contexto es en el que hay que situar la actuación de la ertzaintza y en ese contexto es en el que hay que situar también

el hecho en el que resultó herida en la mandíbula

inmediatamente solicité que se investigara todo lo ocurrido y es lo que se está haciendo ahora es lo que se está haciendo desde el primer momento el servicio de asuntos internos de la

a cabo esa investigación una investigación exhaustiva una investigación detallada para conocer de las circunstancias en las que se produjeron todos estos hechos

porque a lo que nos estamos enfrentando es a una víctima creada por la ertzaintza por una actuación que consideramos desproporcionada

sobre las especificaciones técnicas de este material que están utilizando sobre la energía

porque además se lo llevo preguntando desde el dos mil catorce y usted no me quiere dar estos datos en el informe sobre los proyectiles

que son los que ustedes están utilizando podemos leer que a menos de treinta metros con una energía de ciento veintidós julios pueden provocar heridas graves a las personas entre otras estallido de

desgarramiento interno ruptura ósea entre ellas fracturas y estos son los efectos letales de este material que usted

una mandíbula pero yo me pregunto si hubiese impactado diez centímetros más arriba solamente diez centímetros más arriba si no nos estaríamos encontrando en un nuevo caso

es directo sin rebote porque es un material que ustedes dicen que es más preciso se puede disparar a órganos

dijo que no se puede pero lo que pasa es que en esas

sí que se ve que se está realizando un tiro tenso un tiro directo y que está apuntándose precisamente a la cabeza a la cara de la gente estos lanzadores no meten ruido intimidatorio es decir la gente

recibió un tiro directo un tiro tenso dirigido a la cara como hemos podido ver en estas fotografías hay otro paralelismo que también quiero encontrar en el caso cabacas y es la presencia de jorge aldekoa en esta cuestión y se lo voy a explicar él mismo

y le pregunté recientemente a dónde se había retirado y usted me dijo que está en comisión de servicios para el seguimiento de programas y proyectos en cursos de implantación entre otros ámbitos para la modernización de la brigada móvil fue la brigada móvil la que realizó este disparo

este material y yo lo que le quiero preguntar es si

que están generando estas heridas tan gravísimas en este caso en una persona en una mujer joven eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

todo el análisis exhaustivo tiene las conclusiones y no sirve de nada todo el trabajo que se está llevando a cabo trabajo exhaustivo trabajo detallado para determinar cuáles son las circunstancias y valorar cuáles fueron

usted dice que esta persona esta chica esta chica joven sufrió estas heridas a consecuencia que fue la causante y la culpable y la responsable la ertzaintza pero hay una cosa que usted obvia

ahí se produjeron muchos desórdenes se produjeron actos de violencia actos de violencia incidentes que se están investigando tanto los actos de violencia

mitin de vox como también en esa concentración que había hecho de actos de protesta ernai

graves la actuación proporcional fue provocada por esos hechos de violencia por esos actos de vándalos la actuación policial fue proporcional para tratar de atajar los hechos violentos que se estaban dando

adecuada a las circunstancias en las que se estaban produciendo la instrucción setenta y cuatro regula el uso de los lanzabolas es muy explícita

que contiene está orientada precisamente a evitar o minimizar las consecuencias no deseadas para la vida y la integridad de las personas los agentes conocen las normas y tienen formación específica en el uso de esos materiales antidisturbios

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señora otamendi en primer lugar debo aclararle que si bien el departamento de trabajo y justicia tiene competencias

en procesos de negociación colectiva siempre que las partes sindicatos y patronal lo soliciten es evidente que el asunto que hoy nos ocupa no entra en ese supuesto y en todo caso

a lo que se me ha preguntado y cuál está siendo nuestra intervención en este asunto referido a la autoridad portuaria de pasaia

breve y concisa en mi respuesta pues como bien dice usted en la justificación a su pregunta

la consejera tapia le dio su opinión la consejera le aclaró perfectamente la situación y realizó un diagnóstico de la misma

la voluntad del gobierno vasco para solucionar la cuestión y es en este contexto en el que se ha producido la solicitud a osalan efectivamente en la oficina del centro territorial

un escrito que se había avanzado por correo electrónico el día uno del mismo mes en el que se expresaba textualmente por la presente como

en el protocolo investigación de tipo psicosocial en curso

dada la actual configuración de los mecanismos que podemos aplicar precisamos de la asistencia de su organización al objeto de poder contar con todas las garantías y su experiencia al respecto esta es la solicitud que se nos hace

sobre el protocolo de tipo psicosocial de la autoridad portuaria de pasaia por tanto queda claro que osalan no está ejerciendo labor alguna de intermediación en ningún conflicto que se pueda estar produciendo en el puerto de pasaia en la actualidad se está trabajando en una respuesta exclusivamente técnica a la demanda realizada en el marco de las funciones asignadas al organismo autónomo osalan

en relación al diseño de herramientas en el campo de los riesgos psicosociales concretamente en el campo relativo a los llamados protocolos de acoso laboral en conclusión no voy a emitir ninguna opinión ni voy a realizar ninguna valoración sobre las posibles
situaciones que se hayan podido generar en el puerto de pasaia eskerrik asko

puedo más que reiterarme en mi respuesta inicial y es que osalan está trabajando activamente

en lo que realmente le compete que es el asesoramiento para que se apliquen las medidas las herramientas más eficaces para la solución del problema una vez definida esa herramienta que se supone que es la más eficaz será competencia ponerla en marcha a quien le competa

y eso es lo que nosotros hacemos desde luego responder a la demanda que se nos hizo en función de nuestras competencias que no son más que dotar de la mejor herramienta

señora consejera egun on hace más de un año que le preguntamos

a usted las razones por las que el pliego de adjudicación del servicio de justicia restaurativa no recogía la obligación de subrogar a las trabajadoras y trabajadores usted

y lo hacía sabiendo que no era cierto tal y como le dijimos en aquella ocasión porque se trata del mismo servicio con otro nombre y por lo tanto hay que respetar

había que haber intentado respetar los derechos de las y los trabajadores y evitar que algunos se fueran a la calle ustedes han hecho todo lo contrario

y efectivamente varias de ellas se han quedado en la calle y además de las peores formas

y entre acusaciones sin fundamento de querer llevarse información sobre los trabajos realizados hasta el momento

sobre los despidos de estas trabajadoras y han sido muy claros el servicio de justicia restaurativa es el mismo servicio que anteriormente se llamaba de mediación

el mismo es más las propias sentencias dan por acreditado que se está en estos momentos haciendo el mismo servicio y que solo ha cambiado el nombre en tres sentencias en tres de tres justo lo que decíamos en este parlamento hace más de un año y que usted se trata del mismo servicio y por lo tanto el pliego tenía que haber recogido el derecho de subrogación usted debería haber velado por los derechos de estas trabajadoras en cambio hizo lo contrario y mintió porque sabía perfectamente que es el mismo servicio por esta razón nosotros le preguntamos por qué omitieron la obligación de subrogar a las trabajadoras por qué ustedes han permitido que estas trabajadoras acaben en la calle y otras trabajadoras aunque estén en la nueva empresa

dos cuestiones bien diferentes que requieren de una respuesta específica por una parte cuestiona una vez más la consideración del servicio de justicia restaurativa con un nuevo servicio de esta administración

el tema de la subrogación de las personas que desempeñaban su labor profesional en el servicio de mediación intrajudicial de manera reiterada he explicado en esta tribuna y en otros foros la diferencia y diferentes objetivos que tienen el actual servicio de justicia restaurativa y su antecesor

he argumentado la importancia y oportunidad de ofrecer a nuestro sistema judicial la posibilidad de avanzar y superar la simple mediación con la inclusión de técnicas como los círculos y las conferencias

instancias internacionales suponen la incorporación al proceso de afectados por un delito o conflicto de otras

esa es la razón por la que convocamos el concurso del nuevo servicio de justicia restaurativa que efectivamente fue adjudicado

con la empresa adosten en el caso al que se refiere usted en régimen de subcontratación también he explicado las razones por las que la administración no estábamos obligados en este caso

del nuevo servicio no obstante y en aras a cumplir con la proposición no de ley aprobada

contacto con la empresa adjudicataria para sin alterar sus derechos de organización

procurar que la mayoría de las personas que habían sido contratadas en el anterior servicio pasaran a formar parte del nuevo equipo sabe perfectamente señor hernández que se ha conseguido el objetivo

no cuestiono yo que sea un nuevo servicio señora consejera es que lo han dicho los tribunales de justicia

hay tres sentencias de los tribunales que dicen que es exactamente el mismo servicio con otro nombre lo que nosotros le dijimos

ocasión y no creo que se hayan cumplido los objetivos cuando hay trabajadoras en la calle trabajadoras profesionales que llevaban diez años y que usted describió como excelentes profesionales

hoy las verdaderas razones por las que estas trabajadoras han acabado en la calle

que ha mentido para tapar un cúmulo de irregularidades en este asunto yo creo que no me van a contestar para no reconocer una gestión una mala gestión en el proceso de adjudicación de este servicio por parte de este departamento controlado por el partido

yo creo que no me van a contestar porque se trataba de dirigir la adjudicación para crear un monopolio privado para la gestión de servicios relacionados con la justicia en euskadi y creo que no me va a contestar porque se trataba de dejar fuera

en el tiempo por parte de responsables de este servicio hay otros trabajadores que están en la nueva

y están sin haber sido subrogados en cambio hay determinados trabajadores que no están y pensamos que lo es porque eran molestos para este chiringuito lo pensamos sinceramente después de haber estudiado bien lo que ha pasado y haber sido prudentes durante más de un año
y creemos que esto es grave señora consejera eskerrik asko hernández jauna

tengo que decirle que el pronunciamiento judicial al que usted se está refiriendo corresponde a una demanda que tenía tres pretensiones

demostrar que el empleador era el gobierno y la que planteaba que había sucesión de empresas

convencional y el pronunciamiento judicial se basa principalmente en que se están utilizando los mismos protocolos que en el anterior servicio de mediación intrajudicial reconozco que eso es así

y coyuntural que está solucionada y que voy con mucho gusto a explicarle

el nuevo contrato la dirección de justicia del departamento tomó la decisión de presentar y consensuar los nuevos protocolos que incluyen las nuevas técnicas de círculos y conferencias al resto de operadores como son la sala de gobierno del tribunal superior de justicia del país vasco a la fiscalía superior y al cuerpo de letrados de la administración de justicia era de rigor hacerlo de esta manera dada la

a tal fin se creó una comisión mixta entre las cuatro partes implicadas que ha concluido su trabajo de análisis de aportaciones a finales del pasado mes de marzo

los casos susceptibles de ser tramitados como círculos y conferencias antes de seleccionarse los mencionados casos y de ser aplicadas las técnicas del nuevo protocolo será enviado a este parlamento

en cuanto al pronunciamiento judicial irse euskadi formulará recurso contra él basándose en la nueva situación

esto afecta al departamento nos sumaremos al mismo eskerrik asko eskerrik asko